defendatzea ere bada todo ello porque cuando en la reforma laboral se incluyen medidas

consecuente centralización de los ámbitos de negociación supone perder uno de los pocos instrumentos que en nuestra comunidad tenemos para regular las condiciones laborales

el día de la interpelación que defender el marco vasco de negociación colectiva es defender también el autogobierno y la labor de las organizaciones empresariales y sindicales vascas y la defensa de este marco vasco de negociación colectiva no se recoge en ninguna de las enmiendas presentadas es más

el diálogo social en el ámbito estatal lo que convierte al diálogo social en nuestro ámbito en una mesa subsidiaria y de escaso contenido que probablemente ayude a entender las ausencias en esa mesa la enmienda del pnv plantea recuperar el equilibrio de la negociación colectiva pero quiero recordar con lo que he dicho antes que el equilibrio que rompe la reforma laboral no es solo el equilibrio empresa sindicato sino también es el territorial y por lo tanto es otro de los elementos de la reforma laboral que deben de corregirse y que ni siquiera se mencionan en ninguna de las enmiendas la pasada semana a preguntas del representante de euskal herria la vicepresidenta tercera y ministra de trabajo en sesión de control se ha vuelto a comprometer con la derogación de la reforma laboral y ha puesto como fecha tope fin de año

nos parece bien pero este compromiso debe cumplirse cuanto antes porque para muchos y muchas trabajadoras puede llegar tarde

en los de la empresa pcb cuyos despidos han sido declarados nulos por una resolución judicial o en las trabajadoras y trabajadores de tubacex en huelga indefinida desde hace más de cien días en contra del ere y en defensa del empleo o de las trabajadoras que ahora quiere despedir hmil

que en la siguiente fase puedan estar blindados ante los ere de mera conveniencia empresarial que promociona la reforma laboral

y por ello nos ha parecido que no es suficiente decir como se recoge en la enmienda de podemos manifestar su respaldo y compromiso con la anunciada derogación nosotras respaldamos la derogación y no el anuncio de que se vaya a derogar

a continuar desarrollando su compromiso de dejar sin efecto la reforma laboral no sabemos cómo se puede seguir desarrollando un compromiso que todavía no se ha cumplido

como reclamaron los sindicatos el uno de mayo es tiempo de cumplir con los acuerdos sobre todo cuando ya ha transcurrido un año desde que se firmó el compromiso con euskal herria bildu para

es verdad que hay que recuperar derechos que fueron suprimidos y hay que incorporar otros nuevos pero sobre todo lo que hay que es repensar un nuevo modelo de relaciones laborales del siglo veintiuno un nuevo modelo de relaciones laborales que está atravesado por grandes retos como son la transición ecológica la transición digital y la transición

el otro día después de oír a la consejera creo que las diferencias no están en el diagnóstico de la situación de empleo de hecho compartimos básicamente el diagnóstico que se recoge en la estrategia vasca de empleo dos mil treinta desde el inicio de la pandemia sabemos que vivimos tiempos de incertidumbre aún mayores para el empleo para lo que va a ser más necesario que nunca

políticas que antepongan las personas frente al mercado y que además las protejan ante la pérdida y o falta de empleo

no es que lo pensemos nosotras lo pensaban también ustedes en el dos mil diecisiete y así quedó ratificado en un acuerdo firmado en este parlamento con los grupos que sostienen el gobierno

oportunidad para transferir las políticas pasivas de empleo nos dijo que era una prioridad que se había establecido el ejecutivo porque estas políticas engloban aspectos claves para mejorar la calidad del empleo hablaba de una demanda histórica del ejecutivo vasco en fin nos lo tendrán que explicar hoy sobre todo ustedes los señores y señoras del pnv

renuncia y de las gordas porque en ninguna de las enmiendas se recoge la necesidad

ha dicho formaba parte de una reivindicación histórica del movimiento sindical vasco y también como se ha reconocido del propio ejecutivo de los gobiernos

de preocupación sobre todo respecto de la oposición del pnv si es que

y después de haber sido conscientes de la esencialidad

de esa misma clase trabajadora para el mantenimiento de la sociedad y de la economía escuchar la voz de las y los trabajadores a través de sus sindicatos de clase

plasmar una respuesta positiva de este parlamento a sus mensajes del pasado primero de mayo nos parecía una buena propuesta política

de primer orden por parte de este parlamento la implementación de las políticas impulsadas por el capital en nuestro país a partir del año dos mil diez

durante muchos años con sus luchas en concreto esa ofensiva se plasmó a través de las reformas laborales

la especialmente dura del año dos mil doce del partido popular pero también con la reducción generalizada de los salarios con la agresión

y con la criminalización de las luchas obreras y la actividad sindical de trabajadoras y trabajadores durante el tiempo de confinamiento

vivimos la que tal vez fue en mi opinión

y los trabajadores cuando millónes de personas salían a aplaudir a sus ventanas a las ocho de la tarde primero a las y los profesionales de la sanidad pública pero poco a poco a las y los trabajadores del resto de servicios públicos para finalmente reconocer también

cajeras de supermercados repartidores de comida a domicilio y así poco a poco a trabajadores de otros muchos sectores se visibilizaba algo que nunca ha dejado de ser una realidad sin la clase trabajadora no hay nada sin la clase trabajadora no hay economía

ni servicios públicos ni nada de nada tenemos por lo tanto en nuestra opinión como sociedad una deuda con la clase trabajadora que exige pasar del reconocimiento moral o formal de esos aplausos

efectivo a través de la transformación de un mundo del trabajo caracterizado en estos momentos por la precariedad a uno que se caracterice por el empleo decente estable con derechos y bien remunerado y eso no se va a poder hacer si no se cambian

basadas en una desigual correlación de fuerzas entre patronales y trabajadores las políticas que busquen garantizar la calidad en los empleos no pueden negar esto ni de manera deliberada ni de manera

porque la precariedad laboral no responde a la casualidad ni a inevitables fenómenos la precariedad laboral la pauperización de las condiciones de trabajo y de vida de las y los trabajadores que hemos conocido en la última década tiene responsables

a intereses del capital intereses que han venido pasando por encima de las condiciones de trabajo de vida de la clase obrera y que se han plasmado también en fórmulas legislativas que han facilitado esto las reivindicaciones planteadas por los sindicatos el pasado primero de mayo

ese objetivo precisamente y lo han hecho además poniendo sobre la mesa las propuestas las cuestiones concretas que han de ser transformadas ese debe ser el objetivo en nuestra opinión de la respuesta que este parlamento deba dar

y los trabajadores este pasado primero de mayo respaldar sus reivindicaciones y sus objetivos si esa era la idea

una buena propuesta hacer esto por parte de este parlamento eso es lo que hemos procurado recoger en nuestra enmienda a la totalidad a una iniciativa que llevaba por título precisamente

en el ámbito laboral formuladas por los sindicatos vascos en relación con el primero de mayo en primer lugar si vemos

se debe cambiar el marco de relaciones laborales para acabar con la inaceptable posición de privilegio que la reforma laboral de dos mil doce otorga a la patronal y los trabajadores se debe recuperar la ultraactividad de los convenios esta es una herramienta fundamental que ha otorgado una ventaja sin precedentes a la clase en este país en las últimas décadas los convenios sectoriales deben recuperar su referencia de mínimos esa es

cuando decía que ninguna de las enmiendas recogía la ruptura de las relaciones también territoriales

que ha explicado ninguna de las enmiendas la recoge tampoco su iniciativa original la recoge como tal porque es parte precisamente de la reforma laboral y creo que su iniciativa como nuestra enmienda plantea esa derogación de la reforma laboral en la que estamos

y que incide precisamente en esto este es uno de los puntos que se deben

de la actual legislación porque efectivamente la mayoría de los convenios sectoriales que por cierto en euskadi la mayoría de ellos son de ámbito

no se firman demasiados es un elemento efectivamente fundamental apostar por acabar con esa reforma laboral es apostar explícitamente también por eso aunque no se recoja de manera más explícita creo que en ninguna de las enmiendas es verdad pero tampoco creo que en su iniciativa original el control sobre los despidos colectivos una cuestión importantísima que estamos viendo en algunos ejemplos

otros como los de tubacex etcétera regular las contratas y las subcontratas una cosa que a veces también se nos olvida pero que también está ahí

de los convenios colectivos etcétera pero más allá también de esta reforma laboral la que nosotros estamos comprometidos

en su retirada no en el anuncio de su retirada pero si no se ha retirado pues yo en este momento no puedo hacer otra cosa pero desde luego nuestro compromiso

en más de una ocasión decir que por la cuenta que nos trae que vamos a cumplir

pero también se deben atender a otras cuestiones que han planteado los sindicatos el primero de mayo subir los salarios eso pasa por la subida del salario mínimo

se debe mejorar el sistema de protección por desempleo porque en el capitalismo no vamos a conocer el desempleo cero tengamos las competencias

siempre hemos defendido desde hace décadas históricamente también en este parlamento o no las tengamos y se deben tumbar las reformas de pensiones

porque también esta es una cuestión que atañe a las cotizaciones de la clase trabajadora de este país pero en segundo lugar también el gobierno vasco tiene un papel fundamental

algo sobre lo que pensamos que en la legislatura pasada no se hizo nada o prácticamente nada con muy poco impulso y velar también porque se cumplan

ha reivindicado que las herramientas que tenemos se deben redimensionar porque el mercado de trabajo que tenemos es una auténtica jungla a la que

a sus desmanes por la falta de recursos no tanto por la falta de competencias en este caso sino por la falta de recursos puestos a disposición de este fin pero también pensamos que el gobierno tiene que tener una actitud activa en defensa de la clase trabajadora en los conflictos y es algo que incluimos

pensamos que ante las reivindicaciones del primero de mayo creemos que también los trabajadores las trabajadoras los sindicatos piden gobiernos que se mojen que se mojen en conflictos

de las relaciones de trabajo de las relaciones de producción y pensamos que una de las reivindicaciones que están también sobre la mesa es la exigencia de gobiernos que se mojen

en falta constantemente también por parte de este gobierno y así se lo hemos dicho

bien por lo tanto nosotros hemos presentado una enmienda que creemos que recoge las reivindicaciones que hemos escuchado a las centrales sindicales este pasado primero de mayo y sobre todo que recoge el común denominador de las reivindicaciones de las diferentes centrales sindicales que se han expresado como todos los años

para que se aprobase una iniciativa de respuesta

termino ya señora presidenta hoy se cumplen noventa años de un hecho histórico en la lucha obrera de este país la matanza de las y los trabajadores

del sindicato de pescadores esta tarde tenemos un acto

prácticamente todo lo que sé de sindicalismo a su abuelo allí le pegaron dos tiros y hoy es el noventa aniversario de aquel hecho hoy es un buen día era un buen día para dar una respuesta positiva a las y los trabajadores aunque no haya un acuerdo
creo que daremos una respuesta a cada uno desde su posición eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta en la víspera del primero de mayo tuve la oportunidad de realizar una pregunta

de mayo y es que para mi grupo y para nuestro partido es una fecha especial porque la primera ocasión en la que la sociedad vasca fue

de euskadi hace ciento treinta y uno años dos años después de que se ideara esta misma fecha por la segunda internacional cuatro años después de que

de la jornada laboral y cuatro años después también de la fundación

agrupación socialista en nuestra tierra lo que nos convierte en el partido con más arraigo en esta tierra este año cumplimos nuestros ciento treinta y cinco años y esa pregunta que formulé en la que hablaba de la importancia del primero de mayo

a la estrategia vasca de empleo dos mil treinta que el próximo lunes vamos a poder discutir y aportar mediante propuestas de resolución tal y como se

pero tal y como también dije el primero de mayo fue también el primer paso para que las causas de los más vulnerables llegaran a las instituciones y que desde las instituciones se plantearan soluciones

los socialistas nos sumamos al primer primero de mayo hace ciento treinta y uno años y la respuesta fue dura pero mereció la pena porque la consecuencia fue la reducción

laboral pero es que los trabajadores vascos con esta movilización tomaron conciencia además de la capacidad de cambiar las condiciones

y trabajaban y lo que es más importante tomaron conciencia de su capacidad de llevar a las instituciones a representantes públicos que pudieran cambiar esas condiciones y dar soluciones a los que eran de verdad a sus problemas hoy los trabajadores y trabajadoras

como es lógico a cuestiones y retos muy diferentes a los de hace ciento treinta y uno años en un mundo en constante transformación y que la crisis no ha hecho nada más que acelerar y los socialistas estamos a eso a dar soluciones comprometidos a fondo en esta legislatura en atender lo urgente qué es el rescate social y el rescate económico de euskadi pero sin desatender lo importante que son

las transformaciones de todo el mundo que nos rodea leyendo la iniciativa

euskadi parece que se quiere trasladar la idea de que no es posible hacer nada de enjundia si no alteramos nuestra realidad competencial

en cuestiones que no están en manos de este parlamento y nosotros no estamos de acuerdo el debate que preocupa a los trabajadores y trabajadoras de euskadi no es el debate competencial

en una festividad tan señalada como la del primero de mayo y muchas de esas reivindicaciones se encuentran dentro de la estrategia vasca de empleo dos mil treinta que este lunes a petición propia

y que como saben también a petición propia va a ser sometido a debate y propuestas de resolución por los grupos parlamentarios y yo creo que es importante que no se desaproveche la oportunidad porque estamos de acuerdo en que en este momento de grandes transformaciones es necesario impulsar un pacto por el empleo de calidad

abierto a todos los agentes sociales y políticos pero es

un pacto para impedir que esas transformaciones y cambios en el sistema productivo aumenten las desigualdades un pacto para abrir una nueva etapa en las políticas de empleo

y la igualdad y un pacto para alcanzar un modelo de mercado de trabajo

y económico sostenible e igualitario de euskadi y que se caracterice por ofrecer oportunidades de empleo de calidad en equidad por la inclusión social y el desarrollo humano y todo esto desde nuestro autogobierno desde nuestra realidad competencial

pero eso no lo vamos a decidir en esta cámara y por eso instamos al gobierno de españa a continuar desarrollando en el marco del diálogo social

y promover una nueva legislación laboral para el modelo de relaciones laborales del siglo veintiuno y a que desarrolle un nuevo estatuto de los trabajadores para ese siglo veintiuno y otras cuestiones que también se recogen en el acuerdo de gobierno que

y unidas podemos y que evidentemente se van a cumplir y otras cuestiones que también se han debatido en este parlamento por ejemplo en el año dos mil diecisiete como señalaba la señora garcia en relación a las políticas pasivas de empleo pero eso tampoco se va a decir en este parlamento ya lo saben donde se debatirá es cuando toque en base a un cronograma acordado entre el gobierno de españa y del gobierno vasco que todos ustedes conocen y por eso

no nos pueden impedir asumir el reto de lo que sí depende directamente de nosotros que es ofrecer hoy no mañana ni pasado y desde aquí desde euskadi desde este parlamento las soluciones que podemos abordar dentro de nuestra propia realidad

que la estrategia vasca de empleo que debatimos este lunes contempla por ejemplo que las políticas activas pasen a ser un derecho subjetivo al servicio de las personas para completar nuestro estado de bienestar un nuevo derecho subjetivo a la formación y a la activación

sirva para el progreso y la cohesión social de euskadi en euskadi hemos sabido estar a la vanguardia de los derechos y lo hemos hecho con un uso inteligente de nuestro autogobierno tal y como le he recordó la señora mendia hemos sabido transformar competencias en derechos eso

después con el sistema de protección social y más tarde con el de la vivienda hace diez años asumimos las competencias en políticas activas de empleo y hoy lo que proponemos es pasar a transformar esas competencias en un nuevo derecho subjetivo que va a mejorar la calidad del empleo es evidente que tenemos todavía recorrido en mejorar la igualdad

y conseguir nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras y para ello tenemos un compromiso y una herramienta clave la estrategia vasca de empleo dos mil treinta

ese pacto para que gobierne quien gobierne en los próximos diez años tengamos un rumbo fijo en el campo del empleo y esto obviamente apela al gobierno

pero es que también apela al resto de los grupos parlamentarios creo sinceramente que las preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras de euskadi no son los debates competenciales se centran en reivindicaciones laborales y en la demanda de que desde las instituciones sigamos ofreciendo soluciones a los problemas reales

y en nuestras manos está este lunes todos nosotros en el debate monográfico de la estrategia vasca de empleo tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir

sumando en lo que nos une y ofreciendo entre todos las soluciones que los trabajadores y trabajadoras de euskadi nos reclaman yo confío nosotros estaremos a

va a ser la de sumar creo que ese será el mensaje más potente que podamos hacer llegar a los trabajadores de nuestro país nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

garcia presenta interpelación a la sailburu y estructura la misma en tres partes

nos dice algunos tienden a criminalizar la huelga como herramienta

y para ello usted nos recuerda qué es lo que se celebra el uno de mayo yo señora garcia defiendo el derecho

mi derecho a la huelga cuando lo he considerado oportuno en bastantes ocasiones

uno de mayo recordando lo que significa de avance en el ámbito socio laboral pero lo que no hago y tampoco voy a hacer hoy es perseguir sus falsos señuelos

que coincide con la interpelación que usted registra el diez de mayo zer asmoa du mendia andreak enplegua defendatzeko eta kalitatezko enplegua sustatzeko

consejera y esa es su interpelación

de solicitud de interpelación sino en la propia interpelación que podríamos denominar la interpelación tapada en la que usted pregunta sobre un acuerdo

un acuerdo o aquello que no sabemos muy bien qué es sobre la reforma laboral o algo así

me referiré posteriormente pero como ya sabe nosotros hemos enmendado también sobre esta cuestión para fijar posición respecto a la suya

interpelación a mi juicio usted recibe cumplida respuesta de la sailburu el catorce de mayo durante el pleno de control y el diecisiete

para mí suele ser de gran interés la justificación de las mociones y suele ser una práctica habitual que subrayo en los debates el referirme a su elaboración no es extraño que haya reconocido el trabajo parlamentario que hay detrás de muchas de ellas

a su grupo especialmente y reconozco que también lo hago para buscar ciertas contradicciones su justificación esta parlamentaria interpeló a la consejera nos dice

la respuesta que se le dio presenta la siguiente moción en este punto yo tenemos un primer debate entre nuestras posiciones lo que para usted es una respuesta

consejera para mí es una notable respuesta no sé si usted escribe esa justificación como un automatismo para ir rápido a la moción o tal vez no entendió la respuesta de la sailburu en cualquier caso creo que

usted pregunta qué va a hacer le pregunta qué va a hacer y ella le responde voy a hacer todo esto voy a hacer todo esto en el ámbito del empleo todo esto junto con ustedes y se sintetiza

y usted le responde por escrito una respuesta insuficiente vamos a ver me valdría cualquier argumentación desenfocada no ajustada pero insuficiente considero que es poco serio

de la moción que hoy nos trae aquí porque a la pregunta que usted le hace el qué va a hacer la sailburu le responde

el gobierno vasco se ha hecho muchas otras preguntas además del qué vamos a hacer se han preguntado quién quiénes van a participar dónde van a intervenir cuándo por qué cuánto y al menos dos cómos

y otro el cómo metodológico previo el que vamos a poner en práctica estos días el cómo de la aportación de todas y todos nosotros en el debate monográfico que a mí me extraña que usted diga de esto de la estrategia no podemos decir nada porque todavía no se ha debatido oiga que nos han dado el texto algo podrá decir

la parte principal de su interpelación señora garcia

amplia y que yo calificaría de completa todo lo contrario a su

respuesta insuficiente y no solo le responde de forma notable

y todos los que estamos en los escaños de esta cámara a avanzar en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores pone a nuestra disposición esta estrategia y nos apela a través de la negociación

ya adelanto que en nuestro grupo parlamentario aceptamos esa invitación del gobierno y nos presentamos a realizar ese ejercicio de aportación

personalmente también me impulsa a participar el tener la experiencia única de haber colaborado en la elaboración de la anterior estrategia de empleo

nos llega este nuevo mazazo por ello me presto a colaborar con mente abierta pero con convicciones claras porque para mí la política de empleo es una de las políticas

también por lo que significa de posibilidad de desarrollo personal colectivo ese empleo de calidad como medio que permite desarrollar el potencial

porque el empleo ese empleo de calidad inclusivo que quiero es un instrumento fundamental para que nuestras empresas puedan desarrollar todo su potencial y aportar

y ello desde su compromiso con la sociedad y en el marco de un desarrollo sostenible esta estrategia que el gobierno nos entrega

una visión de lo que necesitamos las personas trabajadoras de euskadi y una visión de lo que necesitan las empresas vascas para salir de la mayor crisis que hemos conocido

en esta cuestión también tenemos una clara diferencia de enfoques señora garcia usted nos dice y le voy a citar resulta difícil

de las políticas de empleo sin contar con nuevos instrumentos resulta difícil bueno punto primero sí tenemos algunas herramientas nuevas como le recordó la sailburu punto segundo vamos a crear más herramientas nuevas como puede ver en la propia estrategia

punto tercero hay herramientas que ya conocemos pero es muy posible que no las hayamos explorado lo suficiente

de esa cita suya es la actitud me suena un poco a hasta que no tenga todas las herramientas no me pongo a trabajar

a qué me recuerda esto la escasez de herramientas ha sido una constante en la evolución

a la superación de esa situación se le llama ingenio tenemos herramientas señora garcia tal vez no todas las que nos gustaría tener pero tenemos herramientas y la más potente de nuestras herramientas

me preocupa ese derrotismo táctico que parece transmitir usted bueno pues yo solo le diría ante eso que en otras ocasiones lo hemos hecho

a pesar de todas esas dificultades y estoy seguro que en esta lo volveremos a hacer apúntese señora garcia apúntense no hay que negar que los efectos de la crisis generada por la pandemia sobre el empleo han sido importantes

que hay previsiones de recuperación para euskadi que nos alientan la acción política desde las administraciones públicas va a ser determinantes si queremos salir de esta grave situación sin dejar a nadie atrás que es el objetivo el gobierno

el gobierno nos invita nos apela a participar para mejorarla aún más nosotros nosotras nuestro grupo parlamentario

la situación de desempleo efectivamente es insostenible y la covid ha tocado todo nuestro sistema productivo generando problemas que en muchos casos han sido insalvables

los motivos son muy claros se han dedicado a cargar contra la reforma laboral del dos mil doce y se dedican a pedir empleo público y más empleo público como si esta situación la que tenemos ahora lo permitiera en esta crisis en la que estamos inmersos

han demostrado tener una doble vara de medir sin parangón en el resto de europa tal es la situación que no han convocado ni una sola huelga general a pesar de que llevamos nueve meses en estos y en los demás parlamentos también españoles criticando

vasco para vox los sindicatos a los que se refiere esta iniciativa

ya no cumplen las premisas para las que fueron creados no representan a los trabajadores a todos sino que se comportan como transmisores de los partidos de izquierdas una izquierda que dicho sea de paso ha olvidado por completo los intereses de los españoles de todos los españoles

bien sean empresarios por el contrario se ha puesto al servicio de las élites globalistas unas élites en cuyos planes

el control de nuestro modo de vida y la imposición de sus creencias en definitiva desde vox décimos no a esta iniciativa y también no a los sindicatos tradicionales
donde encontrarán a vox es en la defensa de los españoles de todos los españoles y creo que ustedes no están en ello muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

buenos días señorías se propone hoy a esta cámara que realice una declaración cuyo núcleo es la solicitud de la derogación

puesto que se trata de una decisión que corresponde al congreso de los diputados y no es que sea un problema el que este parlamento inste

esto me parece que sí que cabe el instar a cualquier sitio pero

para una reivindicación del cumplimiento de un acuerdo entre dos socios en madrid y es que como ya se ha dicho el pasado veinte de mayo se cumplió un año del acuerdo firmado

se acordó derogar la reforma laboral y parece evidente que esta propuesta tiene el objetivo de reclamar al partido socialista el cumplimiento de este acuerdo es decir

del que debería hacerse en el congreso de los diputados pues bien señora garcia hagan ustedes en madrid la reclamaciones a sus socios que consideren oportunas y no utilicen las instituciones vascas

y que sigue sin cumplir que el señor sánchez a cambio de su apoyo que tan rentable les ha salido le prometiera a su partido con nocturnidad y alevosía la derogación y otro montón de prebendas

y no haya cumplido ninguna de ellas es su problema no el de esta cámara nuestra posición sobre el tema de fondo

es que no tiene sentido no tiene sentido pensamos derogar una reforma laboral que fue solicitada por la unión europea y que sentó las bases

e introdujo aspectos relevantes que han sido cruciales para mantener el empleo durante la crisis del covid como por ejemplo los erte no sé qué hubiera sido de nuestra economía

imprescindible en una situación como esta y me gustaría oírselo reconocer porque es justo

hay que decir que no es cierto que haya más trabajadores en ere debido a esta reforma laboral en los últimos treinta años por ejemplo el año con más trabajadores en ere fue dos mil nueve con cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y nueve trabajadores en españa en dos mil doce año en el que entró en vigor la reforma

y en dos mil diecinueve un ochenta y siete coma cinco por ciento menos con estos datos no creo que se pueda mantener la afirmación de que la reforma laboral ha generado más ere y la derogación tampoco tiene sentido

así no se avanza así no se construye así no se funciona en europa pero sí que estamos de acuerdo en que el mercado laboral necesita reformas lógicamente

y apoyaremos las reformas necesarias para mejorar la ley pero con los pies en la realidad y la mirada en el futuro y no en el pasado estamos de acuerdo en que es necesario

permanente que no hace más que destruir por una actitud de colaboración

y esas actitudes nuevas hace falta cambiarlas por parte de la administración pero también por parte de

y pensamos que desde este parlamento deberíamos ser capaces de impulsar estos cambios estamos de acuerdo también con el informe de recomendaciones del semestre europeo

son tres la alta tasa de desempleo juvenil la alta tasa de temporalidad y la alta tasa de paro estructural somos los líderes europeos en paro juvenil

del diecisiete coma siete es decir menos de la mitad el paro juvenil

y gracias a la reforma laboral se situó por debajo del treinta por ciento por supuesto que no es suficiente sigue siendo una cifra escandalosa pero la solución no es volver a las políticas anteriores si no en seguir aplicando reformas en este sentido hasta conseguir el objetivo

el número de trabajadores con un contrato temporal era del treinta y cuatro coma cinco por ciento

era el veinticinco coma nueve de verdad que la solución que aportan ustedes para solucionar la temporalidad es volver a modelos que generaban más temporalidad

y respecto al paro estructural en dos mil doce antes de aplicar la reforma

prácticamente el veinticinco por ciento mientras que ahora sin contar

y nos sigue pareciendo muchísimo nos queda mucho camino por recorrer pero la solución no es volver a fórmulas pasadas

es la llamada componente veintitrés nuevas políticas públicas se llama para un mercado de trabajo dinámico resiliente e inclusivo dicha reforma laboral está compuesta por once reformas y siete propuestas de inversión en nuestra opinión se propone una mezcla de reformas con buenas intenciones pero poco concretas y algunas contrarreformas que deshacen mejoras ya hechas y exigidas por europa

solo en buenas intenciones nos referimos por ejemplo a la reforma seis consistente en convertir los erte en un instrumento de flexibilidad permanente

o a la reforma cuatro consistente en simplificar los contratos a tres tipos

muy válidas pero como hemos dicho se quedan en las buenas intenciones respecto a las contrarreformas hay que mencionar la reforma cinco

que tan malos resultados ha dado en todas las comunidades autónomas y especialmente en andalucía con las tramas de corrupción asociadas al partido socialista

la ultraactividad de los convenios y la prevalencia de los convenios de empresa que tengo la sensación de que es el núcleo duro de la derogación con el fin de devolver a los sindicatos su fuerza y que con ella

por encima de los intereses de los trabajadores o de las empresas

y consideró que debían considerarse como parte de las condiciones laborales propias de los trabajadores que habían estado sujetos al mismo lo que anulaba en buena parte

que resulta preocupante la falta de ambición por crear empleo joven

dotados con ciento veinte millónes de euros nos parece una inversión muy escasa muy por debajo

de veinticinco años actualmente en desempleo en toda españa sobre el plan vasco de empleo dos mil veinte no me voy a extender mucho pero sí que debo decir que la primera preocupación que tengo es que la primera noticia que tuvimos del plan

con una de las consultoras del cartel denunciado por la comisión nacional del mercado de las competencias

de verdad espero que dentro de unos años no tengamos que hablar de este plan como de la oferta para asistencia al programa operativo fse dos mil catorce dos mil veinte hecho

o del contrato por la asistencia técnica de seguimiento y evaluación del plan de empleo dos mil quince por cierto adjudicado a la misma consultora

hablemos un momento del desastre del plan de choque de empleo juvenil recogido en berpiztu inicialmente se nos dijo que iba a contar con treinta y cinco millónes de euros pero cuando nuestro grupo parlamentario pidió detalles porque las cuentas no nos parecían muy realistas ni muy claras se nos informó que la inversión

es decir sin hacer nada ya se había perdido el veintiocho coma ocho por ciento del presupuesto del plan y el año acababa de empezar y claro pasaron los meses

solo se ha ejecutado el cuatro coma seis por ciento del presupuesto en cuatro meses por tanto en este punto tenemos que decirles que tener un plan definir un presupuesto y no ejecutarlo es igual de inútil que no tener un plan pero ustedes sigan discutiendo sobre la derogación de la reforma laboral porque resulta más fácil señalar lo que se está dejando de hacer en madrid

básicos y amplios como para haber podido llegar a un acuerdo y bueno es cierto que el lunes tenemos otra oportunidad para seguir hablando de empleo en el marco del debate de la estrategia de empleo dos mil treinta

básicas e imprescindibles para una estrategia de empleo que se proyecta al dos mil treinta y como he dicho y lo voy a decir ahora más resumidamente es un pacto a favor del empleo de calidad

esto ya se recoge en esa estrategia vasca de empleo el señor rico en su intervención además también lo ha mencionado exigir

laboral para repensar un nuevo modelo de relaciones laborales creo que también

y mantener una reforma laboral en vigor que persigue precisamente lo contrario

una política de empleo integral que exige reclamar políticas pasivas de empleo esto tampoco debiera de ser problemático porque como he dicho existe un acuerdo

legislatura anterior del dos mil diecisiete y el pnv hasta hace poco decía que era una reivindicación del ejecutivo vasco hoy tampoco han dicho nada de eso y había una pregunta clara si es una renuncia y como he dicho antes de las gordas y por último planteamos un liderazgo

con nuevos instrumentos y nuevas capacidades competenciales y no sé pues aquí ha debido de estar el desacuerdo respecto de podemos pues quizás nos ha faltado un poco de tiempo y bueno el señor hernández sabe que el problema no es tanto qué es lo que hay que decidir

porque pensamos que en este siglo también hay que poner las bases para hacer otra transición que es la transición al marco vasco de relaciones laborales y luego respecto del señor

recordarle que no es usted el consejero de empleo quiero decir que aquí ha hecho una intervención

que sí contestó y usted hoy ha replicado ese papel y nos ha privado de saber

y si el problema son las cuestiones competenciales para dar respuesta a los retos importantísimos que tenemos en materia de empleo pues quiero decirle que me parece vamos a decir que cuanto menos insuficiente decir que a ese reto hay que responder de ingenio y con ánimo de superación le he querido entender y entonces no sé en un futuro en el que todo va a cambiar una estrategia de empleo que pretende

de plantear la necesidad de contar con nuevos instrumentos y nuevas competencias en materia de empleo

directa la actualización del autogobierno no forma parte de los retos de este siglo pues bueno esa pregunta

pues que seguramente nos ha faltado tiempo pues seguramente señora garcia

socialista para poder abordar algunos elementos que sí pensamos en los que

un mensaje de respuesta a lo que escuchamos a los trabajadores y a los sindicatos a sus sindicatos el pasado primero de mayo que es lo que ustedes nos proponían

contestar a una cuestión porque si le he entendido bien usted plantea en ese debate entre lo de usted ha dicho qué es lo que se va a decidir o dónde se va a decidir y yo entiendo la importancia que ustedes le dan al dónde se va a decidir agradecemos

lo fundamental es qué se va a decidir en cuestiones de derechos de los trabajadores en cuestión

sobre el dónde de cada cuestión nosotros siempre hemos estado dispuestos a discutir y las políticas pasivas de empleo que es una de las cuestiones a las que ustedes hacen referencia muy explícita

en este parlamento hace muchos años también ha defendido que está de acuerdo otra cosa es veamos qué es exactamente la transferencia de las políticas pasivas de empleo

hemos defendido que ahí las cotizaciones de la seguridad social

que no son propiedad ni del estado ni de la comunidad autónoma son propiedad de las y los trabajadores del conjunto de los países de españa

este estado unas contribuciones de los trabajadores las directas y también las que hacen las empresas que salen del valor del trabajo de los trabajadores

propiedad del conjunto de la clase trabajadora y que tienen un elemento de solidaridad entre ellos también independientemente de dónde vivan pero desde luego ahí estamos seguros que también

podríamos ponernos de acuerdo porque lo fundamental a la hora de dar una respuesta a los sindicatos de clase me parece que además después de escuchados algunos discursos es combatir

en la expresión de la señora martínez y también del señor gil vegas

cuando los presentan cuando los dibujan como una especie de mafias con intereses

hoy eso los sindicatos son los legítimos representantes de las y los trabajadores en este país en alguna ocasión lo he dicho las elecciones sindicales tienen el mismo rango que las elecciones políticas y a los representantes sindicales los eligen las y los trabajadores

el señor gil vegas respecto a los convenios de empresa podemos no estar de acuerdo

sectoriales son fundamentales pero usted acusa aprovecha para acusar a los sindicatos que defienden los convenios sectoriales

precisamente el nacimiento de los convenios sectoriales era para defender precisamente a los trabajadores que más dificultad tienen de estar en los sindicatos

en empresas donde hay presencia sindical en las empresas con más tamaño pero es precisamente todo el montón de empresas y euskadi está caracterizado

para que puedan estar cubiertos por convenios colectivos por lo tanto todo lo contrario los convenios colectivos lo que buscan es la mejora de toda la clase trabajadora los convenios colectivos sectoriales y una cuestión más

que ahora se están utilizando para parar el impacto de desempleo con el covid son una cosa del partido popular ya es conocido los erte ya existían con anterioridad desde el año

lo que hizo fue modificarlos para que no tuvieran prácticamente ningún

por el covid para paralizar la sangría de desempleo

modificaciones que el partido popular ha votado en contra por lo tanto también dígase la verdad para nosotros lo importante hoy

lo hacemos convenientemente eskerrik asko

gracias presidenta bueno en primer lugar yo voy a agradecer el tono de casi todos de casi todos

que como bien acaba de señalar el señor hernández

se pueden arrogar como es la mención que ha hecho

en cualquier caso centrándome en la moción que hoy tenemos aquí yo le quiero hacer algunos matices al grupo proponente ha dicho en su primera

que se ha perdido un tiempo importante porque en noviembre eh bildu trajo una moción en la que hablaba de la idea de pacto yo le quiero recordar

también muy agradable para el debate en lo que no estábamos de acuerdo era en la metodología propuesta que desde el principio dijimos que en la idea de ese

y de hecho nosotros dijimos que estábamos trabajando en traer un documento que se recogiera la estrategia

que recogiera las aportaciones de los agentes sociales y debatirla aquí en este parlamento para incorporar las aportaciones que puedan hacer los grupos políticos la idea de ese pacto ese acuerdo para abordar la estrategia de empleo ha sido una idea constante por los grupos que sostenemos al gobierno y por el propio

es verdad que la tenemos en esta cámara desde hace más de un mes y todos hemos podido tener acceso a ello para preparar un debate que yo espero que sea enriquecedor el próximo lunes yo quizá sea

en este hemiciclo también hay unos cuantos que lo han verbalizado pero yo me quiero quedar precisamente viendo ese debate en positivo en la diferencia entre lo que fue la interpelación y luego la que ha sido la propia moción y lo señala un poco el señor

si uno ve la interpelación que se hizo se planteaba que es lo que este gobierno iba a hacer

se centra en lo que este gobierno no puede hacer en lo que no depende de este gobierno

señora garcia voy a entender que eh bildu valora positivamente algunas al menos de las medidas que en lo que el gobierno vasco puede hacer se han puesto encima de la mesa y yo creo que vamos a tener puntos de encuentro

que por ejemplo en la parte de valoración de la situación de la estrategia hay puntos coincidentes y yo creo que el mensaje más potente que vamos a poder lanzar a los trabajadores y trabajadoras de este país lo vamos a dar en la comisión del próximo lunes

yo creo que este punto de partida que es la estrategia vasca de empleo dos mil treinta que se nos ha puesto encima de la mesa

de que iba a ser de debate para propuestas de resolución de los grupos parlamentarios es en sí mismo esa idea de pacto es esa idea de incorporar desde el gobierno agentes sociales y grupos

de la ciudadanía vasca el mayor número de actuaciones que podamos abordar para dar una respuesta integral que es lo que esperan de nosotros

y trabajadoras yo le he dicho que el punto en el que no coincidimos fundamentalmente en su moción es el hecho

plantear la idea o la duda de que nada se puede hacer de enjundia si no tenemos tales competencias como ya sabe en el ámbito de autogobierno

los parlamentarios y de las parlamentarias y la ciudadanía y allí en base a ese cronograma toca hablar de las cuestiones que están planteadas y también nos dice

absolutamente de acuerdo con la necesidad de la derogación de la reforma laboral para que desde el diálogo social tengamos una nueva legislación laboral

muchas de las cuestiones que ha planteado el señor hernández en su moción es que de hecho están sacadas del programa de gobierno firmado entre el partido socialista y unidas podemos pero con esto a cabo yo le decía que en el primero de mayo los ciudadanos y ciudadanas de euskadi tomaron conciencia de que podían llevar a las instituciones

que representaran soluciones a sus problemas y los trabajadores y trabajadoras de euskadi yo creo que esperan que pongamos soluciones desde nuestro ámbito competencial sin escudarnos en tener que esperar a nada a los problemas que actualmente les están afectando esta estrategia vasca de empleo

y este el lunes creo que será un mensaje muy potente que podemos mandar
a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

señor gil muy brevemente ya le han contestado sobre el tema de los erte

alguien que haya estudiado haya sacado con suficiente derecho el trabajo ya lo sabe y de esa cuestión ya hemos hablado con lo cual otro día si quiere hablaremos señor hernández niveles de exigencia

gobierno del estado gobierno vasco gobierno del estado gobierno vasco siempre ha mantenido niveles de exigencia

altos considero hoy al gobierno vasco le decía no ha hecho nada en la anterior legislatura en materia de empleo pero veo que el nivel de exigencia al gobierno del estado está decayendo un poco

cuando viene como la última comparecencia de tubacex pone cara de penitente vamos tarde año y medio

pero a ver si podemos hombre yo creo que mantenga los niveles

autoexigencia señora garcia

usted dice de lo que quiere hablar yo no tengo ningún problema para hablar de ninguna cuestión usted pone los márgenes del debate

y luego en el debate sobre la marcha va sacando otras cuestiones no tengo ningún problema en a lo que me ha dicho a lo que me ha preguntado directamente de hecho me parece vale

se olvidan ustedes de la actualización del autogobierno no nos olvidamos es prácticamente una obsesión no nos olvidamos

las políticas pasivas mire y casualmente tengo un acuerdo que se firmó en este parlamento el uno de marzo

inmediata transferencia de las competencias en materia de seguridad social conforme al dieciocho punto dos del estatuto de gernika yla disposición

pastor el señor hernández y yo mismo no está la firma de su grupo sobre la reforma laboral

nosotros ya tenemos nuestra posición derogación sí también está casualmente en este acuerdo el punto segundo derogar la reforma laboral del dos mil doce al objeto de

las nefastas consecuencias para la calidad del empleo porque tenían

en el sistema de pensiones no está su firma es cierto que votaron a favor pero no está su firma por qué no está su firma eso se tendría

no está su firma porque ustedes estaban a otra en el dieciocho ustedes estaban a otra

y nos hablan de un texto que tienen el marketing al texto yo tengo este texto de marzo del dieciocho

sobre una cuestión en su interpelación y nos dice se me hizo la luz es que lo de allí

se hizo la luz ya no hablo del dieciocho

en el dieciocho también hoy que se ha hablado de hitos históricos

elecciones legislativas en el estado del veinticuatro de febrero de mil novecientos dieciocho hace más de un siglo los que

por favor a qué estaban volviendo al empleo

no está su firma aquí podía estar la firma de la señora

no está sí era una iniciativa

que se unieron en su día volviendo al tema del empleo

necesidad de darle al empleo prioridad en la agenda política necesidad de darle al empleo prioridad en la agenda política supongo que usted se refiere al manual nagore alkorta

vinculadas al empleo ya simplemente para terminar ánimo nos decía también ánimo a los que luchan por el empleo

y lucharemos por el empleo eskerrik asko aiartza jauna

y creo que el debate ha puesto de manifiesto la necesidad de superar esta dialéctica de confrontación y

para construir para proponer de forma constructiva

sobre este tema del empleo nosotros como ustedes saben apostamos por el contrato único un nuevo contrato estable e indefinido que proteja a los trabajadores y ayude a acabar con la precariedad laboral porque muchos españoles viven con contratos basura y sin protección jurídica suficiente

sin tener que estar encadenando contratos temporales nosotros apostamos por el apoyo a los emprendedores capaces de crear empleo nosotros apostamos por la mochila austriaca

en una cuenta durante toda su carrera profesional de manera que en caso de despido o jubilación

esa cantidad acumulada o bien llevársela consigo si cambia de trabajo apostamos por el apoyo a los autónomos y a las pymes apostamos por la reducción de cargas fiscales al empleo es contradictorio que estemos diciendo que hay que acabar con el paro

y apostamos fuertemente por la formación permanente de los trabajadores que garantice su empleabilidad y lo haremos con cheques formación

pero rentable negocio de algunos sindicatos estas son nuestras fórmulas probadas con éxito en algunos países y en algunas comunidades autónomas y para las que ofrecemos la mano tendida

muchas gracias señora presidenta ahora trabajo como profesor

poco a poco fui consiguiendo más trabajos llegando a realizar ochenta y siete bolos en el dos mil diecinueve

la pandemia me ha mudado de piso he vuelto a casa de mis padres estoy cobrando la ayuda

el trabajo ha caído un noventa y cinco por ciento en eventos y un ochenta por ciento

y he tenido mucha suerte al encontrarlo la incertidumbre del sector y sus pocas opciones de trabajo

reanudar mi actividad porque no me aseguran un sueldo digno a final de mes

no me veo incorporándome al sector de los eventos antes del dos mil veintidós

para de una forma más visual haceros partícipes de las condiciones de vida a la que se está enfrentando el mundo de la cultura

creo que estos testimonios son muy clarificadores de la situación en la que se encuentra el sector y como el sistema en que ellos trabajan no cuenta con la protección social necesaria

a pesar de que desde la administración se han intentado e impulsado diferentes tipos de ayudas para paliar el desastre del covid en esta sociedad

la excepcional situación con la que se autorregula el sector cultural ha dado como resultado que muchas ayudas no lleguen

especialmente los trabajadores intermitentes por cuenta ajena que normalmente compaginan

son los que peor lo están pasando este tipo de trabajadores muy específicos del sector cultural y en muchas ocasiones no se han podido

a las ayudas ofertadas no están en erte porque no están en paro

de pintura de música de lo que toque o son autónomos y se dieron de baja nada más empezar a cancelarse todos los eventos que tenían programados por lo cual tampoco pueden acceder a ese tipo de ayudas según concluye el informe que publicó ayer mismo el observatorio científico de eventos

debido principalmente a la intermitencia de la actividad y por tanto

un cuarenta y siete por ciento no se encuentra bajo la cobertura de protección de ningún tipo de ingresos la cultura que se ha visto abocada a constantes recortes presupuestarios por parte de las administraciones desde el dos mil ocho hoy por hoy

tanto a nivel económico como a nivel de empleo la programación cultural que quedó suspendida por mucho tiempo ha parado decenas de proyectos y miles de personas están

a todos los organismos públicos medidas urgentes el sector cultural

pero cuando la pandemia ha dejado con los brazos cruzados a gran parte de sus componentes este entusiasmo no es suficiente para poder seguir tirando del carro en la cultura

pues lo que antes eran obstáculos salvables se han vuelto a enormes abismos donde

y desde la administración se realizan para salvar la situación esta se ha vuelto insostenible para muchos de sus actores esto esta situación acredita la importancia del acuerdo que hemos alcanzado hoy

para instar a este a que revise los requisitos de acceso a las ayudas que destina el sector incluyendo a los trabajadores intermitentes para que ellos también puedan recibirlas estamos ante un sector con serios problemas estructurales pero con grandes profesionales

y desde aquí seguimos pidiendo y esperando medidas como la base de datos de profesionales de la cultura o el estatuto del artista nos alegra haber llegado a este acuerdo

dimensión política de construcción de comunidad y de convivencia muchas veces invisible pero que es imprescindible tener en cuenta

por eso proponemos otro modelo cultural para euskadi que ponga la cultura en el centro de la vida apostamos por un modelo menos paternalista y mercantilizado y más feminista y ciudadano queremos un nuevo modelo cultural que defienda los derechos de la cultura

que incentive las prácticas culturales en todos los ámbitos desde lo profesional y desde lo amateur que sirva para estimular la creatividad y la experimentación

por eso a nuestro grupo le preocupa el acceso universal a la cultura de toda la ciudadanía vasca

este acceso ha de ser entendido como la posibilidad de formación creación uso y disfrute de la cultura superando todo tipo de barreras tanto materiales como simbólicas y de manera distribuida por todo el territorio pensamos que este acceso ha de ser visto se ha visto seriamente dificultado o directamente impedido

por eso planteamos propuestas tendentes a superar las dificultades coyunturales como el salvoconducto cultural y seguiremos defendiendo medidas como esta en el marco de la ley de gestión de pandemia del covid diecinueve que en estos momentos estamos tramitando en la casa donde entendemos

con una línea específica de ayudas para la adaptación y adopción de las medidas necesarias para ello llegados a este punto

no está siendo convocado por el gobierno vasco no está jugando ningún papel

esa mesa de participación de agentes que se reivindica desde el sector cultural en nuestra iniciativa original proponíamos convocarlo pero esta propuesta no ha fructificado en las

pues desde nuestro grupo parlamentario entendemos que habrá que replantearse su configuración para convertirlo en un instrumento operativo de participación activa de la sociedad civil representantes sectoriales y otros agentes culturales en el diseño de políticas culturales

apostamos por la elaboración de un código de buenas prácticas que refleje las particularidades de los diferentes ámbitos y actividades culturales

necesitamos espacios de encuentro de reconocimiento entre agentes

pero mientras se van poniendo en marcha estas acciones e iniciativas como esta la que hoy hemos conseguido acordar

valoramos mucho los esfuerzos que desde los ayuntamientos e instituciones se está haciendo para que no se cancelen los eventos y se mantenga toda la actividad posible

en atención a las pérdidas previstas por cancelaciones de eventos y festivales de verano que todavía

medidas que comprendan el incremento de la contratación pública el pago por anticipado o inmediatamente después de la actuación o la puesta en marcha de campañas de consumo de actividades culturales por parte de las administraciones poniendo especial atención

de que estas medidas vengan acompañadas de programas específicos de otro tipo más transversales que fomenten el empleo de calidad en el sector cultural

contra la brecha de género las personas jóvenes que quieran hacer de la cultura

para ello en este parlamento reconocimos a la cultura como un bien esencial y en este sentido hay que plantear formas de búsqueda activa de recursos

el desarrollo y la aplicación de la ley de mecenazgo y el plan incentivo

específicos de incentivos fiscales de manera coordinada con las administraciones con las diputaciones en este caso todo ello para promover

a la oferta cultural y aplicarlo de forma real y responsable para los trabajos de conservación de enriquecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial

priorizando iniciativas con un impacto directo sobre el entorno inmediato con criterios culturales y equilibrio geográfico en su ejecución lamentamos

no hayan podido entrar dentro del acuerdo que hoy celebramos pero seguiremos dando batalla para concretar tanto las mejoras que hoy acordamos como las que no hemos tenido capacidad de consensuar y por último sí quería agradecer a alerta roja

igualmente a la señora zuluaga y el señor alonso por su predisposición a llegar a este acuerdo muchas gracias a todos

gracias presidenta lehendakari señorías señor angulo bien esta pandemia ha demostrado

de este sector al que usted se refiere el sector de la creación cultural de la creación artística

los espectáculos y todo pues bueno

las restricciones de aforos de horarios de confinamientos de movilidad lógicamente

bastante letal para muchos profesionales del ámbito de la creación cultural y artística

estos meses en este parlamento hemos oído a los trabajadores de la cultura

hacía referencia a ellas y del espectáculo describir su dramática situación y haciendo propuestas a esta cámara

otras instancias que tienen que ver con muchos ámbitos aparte

el ámbito laboral de la promoción económica también el de su reclamación de ese aún

pero no se acaba de concretar cuando fue un acuerdo desde luego absolutamente

la capacidad de todo este mundo que se mueve alrededor de la cultura

tan vivo y rico entre tanto

vasco pero también otras instituciones con

deben de ser en este momento facilitadoras deben de facilitar

cultural la recuperación artística la recuperación de los eventos culturales de los espectáculos de las exposiciones de todo eso que se mueve alrededor

y en ese sentido las instituciones deben de ser facilitadoras y esa función facilitadora se debe de materializar en medidas

en apoyos económicos se debe de materializar en incentivos se debe de materializar campañas de promoción se debe de materializar en canales de información y de programación y eso está claro que hay que hacerlo de una manera decidida señor angulo mi grupo ha hecho simplemente una enmienda de adición a su proposición no de ley porque

en relación con el apoyo al sector cultural con diferentes propuestas y medidas que yo creo eran bastante coherentes bueno algunas un poco desfasadas después de un mes pero bien está claro que tenían que ir por ahí las cosas en relación con la exigencia al gobierno y a las instituciones

yo también pensaba que el bajonazo que daba la de totalidad de los grupos que apoyan al gobierno hubiera subido un poco el tono en una transacción un poco más decidida un poco más comprometida

si podemos hablar de un pasito pues igual es un pasito no pero el bajonazo se ha instalado como en el debate de esta proposición no de ley y la transacción ha quedado en los términos del bajonazo de la enmienda de totalidad usted ha hablado de la palabra que revise pero esa palabra no existe en la enmienda

revisar algunas de las políticas que usted ha hablado no existe en la enmienda de transacción en cualquier caso ahí está si usted la considera un pasito pues bien estará bien o por lo menos no estará

normal desde la presentación de su iniciativa ir abriendo posibilidades también en esa enmienda de transacción que se ofrecía ha pasado un mes es decir hay más posibilidades de abrir

de estímulo a la creación cultural de ir haciendo hacerlo de hecho a través de actuaciones de las que ya hemos hablado también en otras iniciativas y en este parlamento que lo haga también el labi

a lo que es el desarrollo de la cultura del espectáculo del evento

tampoco ha parecido en cualquier caso nosotros presentábamos

una enmienda de adición un punto número seis que yo creo que era muy importante también o sea no nos metíamos en ninguna competencia pero sí que

al gobierno central o como las juntas generales

a las diputaciones forales también porque tienen una importantísima función que cumplir en materia cultural

adopten medidas económicas y fiscales para apoyar a los sectores culturales y artísticos

pensábamos que era una aportación constructiva interesante bueno no ha sido posible también en el bajonazo de la enmienda de transacción a asumirla

sí que hacemos la declaramos desde aquí como interesante ya lo trasladamos además a nuestras juntas generales

dentro de lo que es su iniciativa que también nos ha preocupado porque si algo era fácil

para eso está para asesorar para estudiar para analizar la situación de la cultura en el país y eso se ha retirado de la transacción y eso eso es especialmente grave porque su aportación en la proposición no de ley

si tenían que ser tres meses la redacción de ese informe o tenían que ser seis pero en cualquier caso la participación del consejo vasco de la cultura que para eso está que para eso se ha creado que para eso se reúne o no se reúne para eso o solo se reúne para escuchar las palabras del consejero de cultura

tenía que trabajar y podía trabajar en relación con este tema pues eso también ha desaparecido de la transacción y lo lamentamos porque nos parecía un punto muy muy interesante

pero si es un pasito y usted lo considera así pues nosotros

a favor pero le aseguro que no dice nada nuevo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

egun on guztioi hoy volvemos a traer a esta cámara una iniciativa destinada a impulsar el apoyo a los diferentes sectores de la cultura los eventos y el espectáculo

y sinceramente he de reconocer que me va a ser difícil poder decir algo nuevo en relación a la gran importancia que tiene la cultura

lo he manifestado en diferentes ocasiones cada vez que he intervenido aquí

de repetirse porque la cultura es un derecho es un derecho de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas

en el mundo pero también es un valor fundamental para el desarrollo intelectual y emocional de nuestras sociedades favoreciendo que sean libres y abiertas

porque la cultura en todas y cada una de sus diferentes facetas es el mejor y más eficaz aglutinante social la cultura es la experiencia compartida

que da sentido al sentimiento de comunidad por eso cuando se ve amenazada la cultura

un pueblo que no cuida su cultura que la descuida o que la relega a un papel secundario es un pueblo condenado a un lento

como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y económica derivada

esta pesadilla comienza a hacerse demasiado larga para todos y para todas

medio año ya tuvimos un debate sobre una proposición no de ley traída en aquella ocasión por el señor estarrona de euskal herria bildu sobre la necesidad de consensuar medidas para hacer frente a las consecuencias provocadas por la crisis sociosanitaria en la producción y en las industrias culturales

el escenario en que nos movemos actualmente poco o nada tiene que ver con el de aquellas fechas en ámbito global quiero decir como sociedad

la esperanza comienza a aflorar de nuevo poco a poco parece que vamos despertando de un largo letargo

económica muestran los primeros signos de recuperación en aquella ocasión ese diecinueve de noviembre fuimos capaces de llegar a un amplio acuerdo

la fotografía de aquella votación dejó claramente definidas las preocupaciones de todos y cada uno de los grupos de esta cámara

votó a favor de impulsar y reforzar nuestro ecosistema cultural en un contexto de grave crisis una inmensa minoría siguió ensimismada entretenida y mirándose al ombligo de hecho

todas las instituciones han seguido trabajando a todos los niveles

por primera vez la cultura no ha sido la pagana de una crisis económica el presupuesto del ministerio de cultura y deporte para el año dos mil veintiuno ha aumentado en un treinta y ocho por ciento

además por primera vez la cultura recibe también fondos de europa las industrias culturales y deportivas son políticas palanca del plan de reconstrucción transformación y resiliencia por primera vez también

todos los sectores de la cultura van a recibir ayudas específicas extraordinarias por un valor de setenta y seis coma cuatro millónes de euros de ellos más de treinta y ocho millónes destinados a festivales de música compañías de teatro

asimismo y esto considero que es realmente importante

para los y las artistas de espectáculos públicos y técnicos y técnicas auxiliares de la cultura teniendo en cuenta la que viene siendo una reivindicación histórica del sector

tampoco ha estado parado el señor consejero nos ha venido informando a través de las preguntas para su respuesta escrita realizadas por los diferentes grupos de esta cámara así este año el gobierno destinará más de un millón de euros al sector cultural asimismo

adaptando las herramientas creando nuevas en aquellos casos que se ha considerado necesarios

provocados por una situación de incertidumbre y constante cambio pero las diputaciones forales tampoco han estado paradas en gipuzkoa el programa piztu kultura dos mil veintiuno

de más de cinco millónes y medio de euros se trata de un plan diseñado para paliar los efectos provocados por la crisis de la covid e impulsar la reactivación de nuestro ecosistema cultural

que persigue reivindicar el valor de la cultura como bien esencial para la transformación la mejora social y la convivencia así como sector que aporta riqueza y empleo al territorio

las convocatorias para gasto corriente inversiones y desarrollo de eventos culturales adaptados lógicamente a las necesidades preventivas de la covid ascienden casi a medio millón de euros

y activar la demanda y habría que seguir en ese listado de instituciones en ese repaso sumando también la importante labor que han venido realizando los ayuntamientos desde los más grandes hasta los más pequeños por seguir manteniendo viva la actividad cultural de sus pueblos

ninguna institución ha estado parada este parlamento va a seguir impulsando aquellas iniciativas que ha considerado necesarias para el refuerzo de la industria cultural

el gobierno vasco las diputaciones forales todos y cada uno de los ayuntamientos el esfuerzo por tanto ha sido es y debería de seguir siendo compartido

hemos vuelto a lograr un amplio consenso quisiera agradecer a la señora zuluaga del partido nacionalista vasco su trabajo de coordinación junto con el señor angulo de elkarrekin podemos izquierda unida para lograr un acercamiento entre las iniciativas originales entre la iniciativa original y la enmienda presentada por los grupos socialistas vascos

es necesario enviar al sector un mensaje claro estamos en lo que tenemos que estar una transaccional en la que instamos al gobierno a seguir reforzando al sector cultural a través de medidas económicas dirigidas a paliar las pérdidas causadas a consecuencia del contexto de crisis sociosanitaria en la que estamos inmersos asimismo le instamos a que siga impulsando

que tienen competencia en la materia la programación y celebración de eventos y espectáculos culturales finalmente que mantenga la coordinación

y con el sector el diálogo la información y la participación y sustento de las políticas culturales ojalá podamos superar definitivamente los debates sobre el impacto de la covid en nuestras vidas en nuestra sociedad en nuestra economía y en nuestra salud nunca olvidaremos estos largos meses y todo

eta arriskuak hartu behar ziren esta es la situación que todos conocemos pero cómo se ha reaccionado ante esta crisis en el ámbito de la cultura qué medidas extraordinarias se han adoptado y deben seguir adoptándose que es el título de la iniciativa

inició su andadura esta legislatura con una rápida convocatoria de ayudas al sector siendo prácticamente de las primeras ayudas que se activaron con carácter general por el gobierno vasco desde entonces el departamento ha seguido convocando ayudas y al mismo tiempo

adaptándolas a las necesidades reales del sector en función del permanente análisis de la situación ayer mismo en la comisión de cultura

dio detallada cuenta de toda la financiación disponible para el sector cultural y no voy a repetir cifras

dos millónes de euros más que el pasado año en financiación para la cultura para esta rápida reacción

a través de las mesas ya existentes y a las que como consecuencia de esta situación se han ido incorporando otros actores previamente a la declaración del estado de alarma este departamento tenía articulada una mesa de las artes escénicas con el fin de poder trabajar diferentes proyectos de carácter transversal con este sector así mismo en el sector de la música había una única plataforma que aglutinaba a todas las asociaciones y al iniciarse la pandemia

incorporaron más actores que no estaban integrados todo esto además de otros canales abiertos en otros ámbitos y sectores de la cultura la pandemia

aspectos y situaciones que al llegar la crisis han resultado un serio problema sectores profesionales grupos

que han visto ahora la necesidad de estar asociados o estructurados y después la importancia de la coordinación primero entre ellos y después con las instituciones si algo positivo ha traído la pandemia quizás ha sido esto es triste que haya sido ahora pero desde luego

que el sector cultural ha visto la necesidad de asociación y coordinación sektorearen arazo zehatzak koordinatzeari eta ezagutzeari esker

iristeko el objetivo ha sido mantener toda la creación y actividad cultural posible que la situación sanitaria permitiera

el departamento ha mantenido e incrementado las subvenciones que constituyen una de las principales herramientas de apoyo al sector las convocatorias de subvenciones anuales para la creación y producción cultural ha activado líneas especiales de financiación para paliar la caída de ingresos

han sufrido primero por las cancelaciones y después por la falta de actividad

en activar una línea de ayuda desde lanbide siendo referencia para otros gobiernos gainera beste laguntza lerro batzuen artean sailak kultura erakunde traktoreei

pero este sector como cualquier otro lo que quiere es trabajar no tener que estar pendiente de la financiación pública el sector cultural está acostumbrado al trabajo

muchísimo mayor si cabe el trabajo propio de la actividad y además el que exigía adaptarse a las diferentes circunstancias según evolucionaba la pandemia hoy si uno entra en la agenda de kulturklik por ejemplo son muchísimas las actividades que se están realizando

en bilbao el lunes había tres conciertos dos en el euskalduna y otro filarmónica hay rodajes de películas en nuestras calles tienen que organizar calles y horarios para no interferir hay ferias culturales presentaciones de libros conferencias una actividad amplísima euskadiko orkestrari dagokionez

también pero ya hemos celebrado un primer concierto con seiscientos personas

aún no estamos en los niveles de actividad de antes de la pandemia principalmente por el problema de los aforos y riesgo de concentraciones pero se ha conseguido una actividad cultural

por supuesto del sector y de las instituciones por eso en junio del año pasado y finalizado el confinamiento total se retomó la actividad cultural con la reapertura de cines teatros museos

en vez de seguir reforzando seguir apoyando jartzen duela al sector cultural a través de medidas económicas dirigidas a paliar seguir impulsando y facilitando conjuntamente con el resto de instituciones vascas hau da bigarren puntu hau ere

akordioan inondik inora jasoak izan ez direnak se hablaba de la flexibilización de requisitos de acceso

de la implementación de criterios de buenas prácticas administrativas la incorporación de criterios de igualdad para la asignación de dichas ayudas de garantizar el derecho a la creación cultural la creación cultural como derecho también una cuestión interesante o incluso de validar como salvoconducto las entradas para asistir a eventos y espectáculos al menos dentro del mismo territorio histórico

tenemos un confinamiento perimetral pero no sabemos lo que nos va a deparar el futuro pero esta es una cuestión también que no aparece recogida hablaba usted también señor angulo el proponente de esta

de la colaboración con eudel del lema cultura segura que ha sido solicitado por el sector cultural también o incluso de la convocatoria y ahí se ha centrado más el señor barrio del consejo vasco de cultura para que en el plazo de tres meses

del mismo por eso digo que para nosotras

de avance medidas tasadas que mejoren el sector cultural bienvenido sea porque como se ha visto en las últimas ayudas que antes he mencionado cualquier avance siempre es insuficiente cuando hablamos del sector cultural por sus propias características eta aldiz

presidenta pues voy a empezar diciendo que me gustaría que esta iniciativa

que se hubiera quedado tan desfasada tan desfasada que no serían necesarias estas ayudas a la cultura al covid por qué porque no fueran necesarias sin más muchas de las partes de nuestra iniciativa original se habían quedado desfasadas como

que quitarlas sin más no tienen mayor misterio ojalá no hubieran no sería necesaria ninguna y otras pues bueno como en toda negociación

acepta y se cede pues bueno nosotros hemos cedido parte de ella no creo que sea un pasito ya

la misma réplica no creo que se dé un pasito pequeño en esta iniciativa ni en esta transacción de hecho creo que es un paso bastante bastante grande pues pasamos

de un marco cultural reducido a un marco cultural mucho más ampliado por fin por fin

desde el gobierno se ve que los agentes culturales no son solo aquellos que son los creadores los que están en un o en tal o en cual epígrafe con la transacción lo que hemos es ampliar el marco a muchos otros a muchísimos otros trabajadores de la cultura que hasta el momento se quedaban fuera y que ahora pueden acceder esa es la diferencia y lo hemos aceptado porque era una línea roja ese marco y creo que

dónde el comer es la urgencia las otras medidas las medidas más estructurales las que debería per se dar el gobierno vasco ya sea

o la mesa el consejo vasco de la cultura que deberían reunirlos pues bien soy crítico soy muy crítico con el gobierno creo que ayer lo fui en mis intervenciones cuando le he preguntado también lo he sido

cuando se recoge una cosa buena se dice y este acuerdo es bueno es bueno porque incluye a todos no deja a nadie no solo a dos

sobre el lema cultura segura y sobre el impulso a los eventos

es un lema que el propio sector a veces rechaza porque da la impresión de que su problema ya está solucionado no el problema no está solucionado falta mucho y falta como he dicho

impulsar mucho otra vez todos los eventos todos los espectáculos todas las fiestas más conciertos más teatro muchísimo más

y respondiendo más exactamente al señor estarrona nunca dejo

y de los creadores y creadores vascos y lo menciono en el texto
hablo de nosotros siempre sin más mila esker eskerrik asko angulo jauna

gracias presidenta consejero consejera señorías bien volvemos a hablar en este parlamento de la

hemos visto en este año y medio último quiénes son las personas

desde el punto de vista de la salud han sido claramente las personas mayores y lo hemos visto desde luego este

y dolor también hemos comprobado y hemos constatado

que hay que avanzar en la atención a este colectivo en los cuidados sanitarios a este colectivo lo hemos comprobado lo hemos constatado

desde luego nos ha convencido de que hay que dar pasos en relación con el cuidado

a los mayores en el ámbito sanitario y desde luego en muchos otros la población geriátrica es un sector creciente desde un punto de vista demográfico pero debido al sobreenvejecimiento de la población es aún más creciente

hemos de afrontarla como un logro social buscando soluciones acordes con la demanda y con el nivel de vida de nuestra sociedad las personas mayores tienen unas necesidades de salud

que la geriatría es una especialidad médica y de enfermería orientada a la atención de las mismas ni más ni menos esto ya lo decía hace bastantes años el

congreso las especialidades médicas y de enfermería geriátrica se están imponiendo

sociedad actual en la medicina moderna en el tratamiento de las enfermedades en los distintos sistemas públicos la medicina moderna se está convirtiendo en estos momentos

en esencial y nosotros consideramos que esta implantación desde luego tiene que ser en euskadi y es aún una asignatura

que mi grupo cree que se debe de resolver en esta legislatura y además cuanto antes está claro que en palabras de la famosa geriatra

los geriatras utilizamos como principal herramienta de trabajo la valoración geriátrica integral en la que tenemos en cuenta

médicos del paciente sino también su situación funcional capacidad de realizar actividades de la vida diaria cognitiva cómo está su memoria sus capacidades cerebrales su situación anímica y social y la social efectivamente si vive solo o no sus redes familiares sociales la necesidad de apoyo por eso decía la doctora fernández larramendi ofrecemos por tanto una visión holística y centrada en el paciente para conseguir

autonomía y calidad de vida posible pues este es el fin desde luego que se persigue con esta cuestión tenemos que decir también y

unidades acreditadas docentes ya en la mayoría de las comunidades autónomas es decir castilla la mancha castilla y león me refiero a unidades acreditadas docentes para la formación

canarias asturias aragón islas baleares es decir y ahí está precisamente el esfuerzo que se va haciendo

confiamos y esperamos que se haga inminentemente también en el país vasco ahí están los elementos normativos que lo regulan la orden de dos mil nueve por la que se el programa formativo de la especialidad en enfermería geriátrica ahí está desde el dos mil uno

otros compromisos del gobierno vasco del gobierno vasco en aquel momento en relación incluir a la geriatría como especialidad médica desde luego está reconocida en españa desde hace cuarenta y tres años como especialidad mir ya desde mil novecientos setenta y ocho

todavía parece que hay una desconfianza en la especialidad de la geriatría en este país y desde luego ha sido gracias a la medicina

a la sanidad privada la geriatría es una realidad en el país vasco pero también a la sanidad privada aquí

y nuestras geriatras y nuestras enfermeras geriátricas han ido a trabajar desde luego a otras partes de españa es decir ese es el elemento fundamental nosotros hemos presentado una moción que fue la consecuencia de la interpelación que tuvimos

la situación y las circunstancias donde pedimos que el parlamento vasco al departamento de salud del gobierno vasco a incorporar especialistas de geriatría

y asimismo desde luego complemento necesario

a facilitar las condiciones necesarias para desarrollar y organizar la formación de especialidad de geriatría en la comunidad autónoma vasca es decir

no hay geriatras en la sanidad pública y desde luego eso pretendíamos nosotros incorporar yo quiero decir que

la moción que se aprobó en dos mil nueve en esta cámara en dos mil nueve se aprobó una moción tal como esta el parlamento vasco insta al departamento de sanidad y consumo del gobierno vasco

allá donde se considere más idónea y oportuna su función de acuerdo con el estudio que se presentará en el parlamento vasco en el plazo de seis meses de acuerdo con la estrategia de atención multidisciplinar dirigida a los cuidados de los enfermos crónicos

poder desarrollar y organizar la formación de especialidad de geriatría

muy clara ya vuelvo a decir hace doce años en este

partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi hoy quienes conforman el gobierno de la comunidad autónoma vasca y quienes tienen las responsabilidades en la materia sanitaria o sea que en aquel momento ya se estaba produciendo ese importante pronunciamiento por parte de esta cámara yo tengo que decir

han seguido existiendo las intervenciones de los consejeros las respuestas han seguido

con abrir la puerta con facilitar pero esta no se ha producido ya en dos mil trece cuando se analizaba que no había geriatras en la red pública

que la previsión de la revisión del decreto de puestos funcionales para la adecuación a las nuevas necesidades organizativas permitirá analizar la conveniencia de incorporar el puesto

o sea permitirá incorporar el puesto funcional de geriatra

y pluripatológicos análisis en dos mil trece es decir en dos mil trece la valoración y el análisis la reflexión ya estaba hecha es decir y entonces lo que había les queda reformar ese decreto

desde luego el consejero de salud y también en el dos mil quince y también en el dos mil quince el consejero de salud es

decía que para abordar dicha revisión se viene realizando una reflexión en aspectos relacionados con las necesidades y tipologías de los puestos de osakidetza pueden requerir del caso este sobre la geriatría y gerontología es decir ya estaba también instalada en dos mil quince

de esta respuesta y de esta cuestión o sea que en ese sentido entendemos que ya es hora ya es hora de la incorporación de los geriatras en sus múltiples especialidades en sus diversas especialidades de los especialistas en geriatría en medicina enfermería a la red pública

se recuerda también que las propuestas de mejora que se entiende con la incorporación de geriatras

es promover además de la formación en geriatría de médicos de atención primaria internistas conseguir

garantizar la formación de geriatras en el entorno cultural y asistencial en el país vasco habría otras propuestas de mejora dirigidas a la comunidad había otras dirigidas al medio institucional

congresos de muchas de las propuestas que se han hecho por parte de las organizaciones de las sociedades que

se han ido concretando en desarrollar unidades integrales de geriatría organizadas como equipos de soporte o comunidades estructurales

según el caso además de atención ambulatoria desarrollar un programa de mejora de la atención de las personas mayores en los servicios de urgencias hospitalarias mejora de la atención ortogeriátrica

clarificar la tipología de pacientes y las características de las unidades de media estancia claramente de las unidades sociosanitarias continuar con el desarrollo de las unidades de media estancia con criterios de planificación territorial crear una red de unidades multidisciplinares externas en el diagnóstico y manejo de personas con demencia garantizando el abordaje biopsicosocial

de la enfermedad de alzheimer en función de las competencias profesionales de expertos en el manejo de las

el desarrollo de la atención paliativa en todos estos temas es decir un amplio abanico de funciones que desarrollarían desde luego los especialistas

está claro que nosotros hemos tratado de llegar a un acuerdo de facilitar el entendimiento no ha sido posible desde luego mantenemos

que entiendo que tendrá que cumplirse porque es necesario porque está ahí porque es una exigencia y porque este tiempo también

de pandemia ha demostrado que tiene que ser asumido

mayor a través de la geriatría y la gerontología

elkarrekin podemos es interesante su enmienda es interesante y se lo agradezco pero plantea más cuestiones que la incorporación de la geriatría en relación con la

sugiero a la señora gonzález que los traiga a la cámara para que los debatamos también

centrar en la geriatría yo creo que tiene capacidad específica propia para hacer ese llamamiento en este momento al gobierno en relación con su incorporación

es interesante la iniciativa lo que pasa es que no estamos ya para programas piloto ustedes un programa piloto en el hospital de eibar yo creo que tenemos que ser ambiciosos yo creo que ya la incorporación tiene que ser a toda la red tiene que ser a álava bizkaia y gipuzkoa a toda su red asistencial

la iniciativa pero yo creo que el marco tiene que ser mayor y desde luego

los grupos que apoyan al gobierno pues han tenido la típica enmienda

de la organización también en ese ámbito de la reflexión y de la valoración de la formación en su enmienda de transacción

enmienda hubiese sido buena porque no se dice que se van a incorporar los geriatras

que se está haciendo por eso mismo yo creo que es en este momento insuficiente algo nos podrán decir también los representantes del gobierno nosotros por eso y ya concluyo pedimos al gobierno que adopte una decisión

en la red sanitaria pública de los territorios de álava bizkaia

ederragoak izango direla actualmente casi un veinte por ciento

y se prevé además que en dos mil cuarenta la población mayor de sesenta y cinco años pueda ser el tercio del censo total euskal

se acompaña de una elevada prevalencia de personas algunas de ellas frágiles con dos o más enfermedades crónicas como bien

de su propuesta el partido popular son personas que demandan una elevada utilización de recursos sanitarios

el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida

a reflexionar y a modificar las políticas de salud pública porque la esperanza de vida no solo debe servir para vivir más sino para vivir más

y todas sabemos además que el sistema de protección social que se sustenta en parte en la solidaridad familiar y la comunitaria y que recae en su mayoría sobre las mujeres que hemos asumido como propios y no remunerados

buruzko eztabaida gizarteratzeko y en este último periodo el debate de cómo ven mermados sus derechos en lo que respecta a cuidados

son algunos de estos ejemplos el pasado cinco de noviembre el ararteko les dio la razón emitiendo un informe a modo de recomendación general al gobierno vasco sobre la necesidad de reforzar la atención ciudadana en esta franja de edad para evitar efectivamente todas estas dificultades que sufren las personas mayores

en la forma de relacionarse con las administraciones públicas el gobierno vasco está haciendo caso omiso a lo que recomienda y entonces entendemos que se están vulnerando sus derechos pero volviendo al tema que nos ocupa que por cierto revisando

el partido popular registró esta misma iniciativa y se aprobó por mayoría resulta que hace cuatro años ocho años después

el plan de atención a personas mayores donde se aborda la atención integral a la población mayor de setenta años de nuestra comunidad

se presentaba el proyecto de integración de especialistas en geriatría

quizás lo que reclamaban entonces y también ahora es a lo que da respuesta doce años después este proyecto

en el que dicen por ejemplo la atención a nivel hospitalario de las personas mayores se realizan en osakidetza por parte de equipos profesionales de medicina

con un alto grado de excelencia en los cuidados nos parece perfecto si se cumple nos parece perfecto

ante las mayores necesidades de atención de la población mayor y frágil nos encontramos con un sistema sanitario orientado fundamentalmente a la atención de la patología

y no a la prevención y si el objetivo de la geriatría es intentar restaurar la salud mantener independencia física y mental y una buena calidad de vida frente a la mortalidad

y frente al consumo de recursos sanitarios y sociales

si los recursos disponibles han sido los adecuados analizar qué factores han contribuido a que la respuesta sanitaria con esta crisis que estamos viviendo además no haya sido satisfactoria

y las profesionales de nuestra sanidad y por otro lado hay que analizar las políticas de recortes porque en los últimos años ha habido políticas de recortes en sanidad

también en el día a día y que el personal que tiene que realizar su labor lo esté haciendo en condiciones extremas y también esta carencia de especialistas que nos trae esta iniciativa

y el envejecimiento de la población el aumento de la dependencia y de las enfermedades crónicas en el contexto en un contexto como el actual

peligrosísimamente nuestro sistema de bienestar social donde la salud pública y universal son derechos fundamentales se plantean varios retos en la atención a nuestras mayores

hay que cambiar el modelo tradicional sanitario eso está clarísimo que está centrado en curar y en especialidades compartimentadas tenemos que pasar otro modelo más orientado a prevenir a cuidar antes que curar es por ello que desde elkarrekin podemos e izquierda unida para hacer frente a esta situación que sufren nuestras mayores

con nuestra enmienda a reflexionar sobre cómo se ha recortado durante estos años en la sanidad pública y cómo se ha precarizado durante estos años al sector sanitario y la influencia que esto ha tenido en nuestras personas mayores siendo euskadi como ejemplo del tema que abordamos la única comunidad del estado que no tiene reconocida la geriatría como especialidad en toda la cartera de osakidetza izan ere elkarrekin podemos ezker anitza nire

sino también son necesarias esas otras figuras que decíamos en nuestra enmienda y que no es que lo digamos nosotras que lo dicen las asociaciones de personas mayores lo dicen las asociaciones sanitarias necesitamos fisioterapeutas

psicólogas unidades de rehabilitación entre otras zaharren osasuna da gizarte baten

sumar integrar y complementar especialidades apostar por la sanidad pública invertir en sanidad pública porque si no

cómo o quién cuidará de nosotras cuando envejezcamos eskerrik asko eskerrik asko

años incluso pasos encaminados a poder incorporar la figura del o la geriatra dentro de nuestro ámbito asistencial como es el caso de la osi araba

hacia el paciente geriátrico creó una sección específica con la idea de incorporar una asistencia integral

a una geriatra una geriatra en todo osakidetza en serio

los pasos encaminados de los últimos cuatro años pero continúa llegados a este punto desde el departamento de salud y desde osakidetza consideramos oportuno valorar la posibilidad

consideramos oportuno valorar la posibilidad menudo

gracias señora presidenta más allá de la concreta petición

barrio lo cierto es que plantea un debate general que yo creo que estaba muy bien traído y que

desde hace muchos años hemos venido debatiendo en este parlamento en relación a la adaptación a las nuevas necesidades asistenciales para las personas mayores

según va avanzando la edad nos encontramos con un mayor número de situaciones de cronicidad y también de dependencia

en la población más envejecida y como todos sabemos en europa en españa y también aquí en el país vasco

población dentro de esas franjas de edad esta situación no nos ha pasado desapercibida absolutamente a nadie dentro de osakidetza

esta realidad ha sido una constante a la hora de ir adaptando la prestación de servicios para garantizar una asistencia de calidad a esta importante franja de nuestra población el señor barrio recordará en primera persona el importante paso dado a través de la estrategia de crónicos

asimismo posteriormente los diferentes planes puestos en marcha desde aquel tiempo han venido afrontando este reto tal y como expuso la señora sagardui al responder a su interpelación el plan de salud dos mil trece dos mil veinte

que venía a incidir en la necesidad de un modelo de atención basado en el paciente y en su enfermedad y no tanto centrado exclusivamente en la resolución de los problemas de agudos y lo cierto es que la también ha puesto de manifiesto la necesidad de tener que abordar de una manera más específica la atención al paciente mayor algo que se encuentra recogido por cierto en el acuerdo de gobierno suscrito entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco para la actual legislatura

ha sido incorporado dentro de las líneas estratégicas de la actuación del propio departamento de salud como saben tal y como comentó la consejera

el plan de salud dos mil trece dos mil veinte debe ser evaluado para elaborar un nuevo plan que incorporará todas esas reflexiones para impulsar un modelo integral de atención

se recoge en nuestra enmienda de que se considere la posibilidad de ir incorporando especialistas de geriatría o gerontología

en garantizar la autonomía de estas personas pero con todo esto yo creo que no debemos de perder la perspectiva

yo recuerdo a este respecto algo que ya en dos mil nueve

este último le respondió no se puede pensar que la atención a nuestros mayores se arreglará simplemente añadiendo una especialidad u otra en el sistema puesto que es necesaria una solución

hoy tiene aun más fuerza que en aquel momento por eso digo que esto va más allá de la mera incorporación o no de personas especializadas en geriatría o en gerontología en nuestros servicios asistenciales

vivan en sus casas o vivan en residencias de dar un impulso estratégico al envejecimiento activo y promover la autonomía personal y la vida plena y saludable de las personas mayores de seguir garantizando y extendiendo medidas de cuidado no presenciales como la teleasistencia y de muchas otras cuestiones que debemos afrontar desde la propia capacidad de adaptación e innovación de osakidetza frente

muchas de estas cuestiones como saben han sido incorporadas dentro de los objetivos planteados por el departamento de salud para esta legislatura

desde esa perspectiva integral contando con la evaluación de las herramientas puestas en marcha hasta ahora para seguir garantizando una asistencia de calidad a nuestra población

egun on denoi nos planteaba el señor barrio una cuestión primero inicialmente hoy en forma de moción inicialmente en forma de interpelación y a mí al verla en vivo y

las transcripciones me parecía una interpelación clásica con lo cual

seguir en cierta manera la línea de las ideas que

se evidenciaron y diciendo de inicio que tengo una valoración muy positiva de su iniciativa señor barrio y del impulso

reconocido anteriormente el señor rico nos pedía un momento de reflexión usted en su

se dirigía a la sailburu pero nos pedía un momento de reflexión en relación con la asistencia médica especializada y ya bajaba a la concreción y hablaba de esos y esas profesionales muy concretos los geriatras los y las gerontólogos atiende

a la aportación al sistema sanitario y atiende además a la aportación en un escenario como el actual y no se refiere inicialmente tanto al escenario de pandemia que también sino referido al escenario de envejecimiento que es uno de los grandes retos de país

hoy también de la andadura en el parlamento vasco y efectivamente ha tenido una andadura en el parlamento vasco pero que yo creo sinceramente que también ha tenido una andadura en el ámbito del gobierno con la implicación del gobierno y me gustaría citarle

seguir entendiendo que hay esa reflexión en el departamento le decía a la sailburu usted ve necesario vincular a estos especialistas y además nos habla de una progresiva incorporación al sistema público asistencial de salud y

los propósitos del gobierno en este sentido el gobierno tiene voz no a través de la sailburu y la sailburu

después de dejar constancia cuestión que todos conocemos de la alta capacidad de adaptación e innovación

le habla de un elemento clave que a mi juicio es la clave de este debate que es el plan de salud dos mil trece dos mil veinte en concreto una línea estratégica que es la línea estratégica sobre envejecimiento cronicidad y dependencia y en concreto

muy concreta mucho más concreta que es la valoración como hoy se ha recogido aquí también tanto por la señora gonzález por usted mismo por la señora gonzález o por la señora garde todos entendemos que hay una estrecha relación entre cronicidad y

y si bien es cierto que a veces no estamos hablando de un riesgo inmediato para la vida sí sí entendemos que tiene impactos en la misma acorta la esperanza de la misma y condiciona la calidad

contaba la señora gonzález en la misma la sailburu en esa interpelación nos confirma

en esta importante cuestión no solamente por decirlo así estudiando sino trabajando en la práctica y nos pone algunos ejemplos

centrados en servicios de medicina interna que están en evolución

esos pasos concretos en la osi de araba señora garde cuando ha utilizado esta cuestión y digo utilizado ha hecho una pregunta

hace esa pregunta para obtener un carácter

al hacer esa pregunta de esa manera es posible que consiga cierto efecto usted saca de la ecuación algo tremendamente importante que es todo nuestro modelo sociosanitario nuestra comunidad

volviendo al tema técnico que apuntaba al principio

de salud dos mil trece dos mil veinte línea estratégica concreta sobre envejecimiento cronicidad y dependencia y valoración fase de valoración está en una fase de valoración terminada esta primera digámoslo así cambio de ideas le cito

en su interpelación buena respuesta y buena noticia le dice a la sailburu pero tenemos que saber

tenemos que saber para cuándo la cuestión es el cuándo por lo tanto

del momento de esa reflexión definitiva cuentan ustedes cuándo serán las conclusiones del análisis y tal yo ahora en ese momento diría bueno pues es el momento de que la sailburu se centre en el cuándo y

mire el plan de salud dos mil trece dos mil veinte en ese plan de salud debemos evaluar

a su término este mismo año este mismo año

contestada su interpelación pero qué hace la sailburu

le anuncia el impulso de un nuevo modelo integral de atención sociosanitaria no se trata solo porque no se trata solo de incorporar o no nuevas figuras sino de una profunda

de nuestro sistema de atención a las personas mayores vuelvo al inicio

y ahí está el salto cualitativo necesita el departamento necesita evaluar bien dejémosle hacer dejémosles que lo hagan

ese dejar hacer dejar hacer con el cuándo que nos ha puesto la sailburu aun así nosotros hemos enmendado desde el respeto al dejar hacer y en este sentido

especialistas de geriatría gerontología en sus equipos profesionales con el objetivo de proporcionar una mejor asistencia a las personas mayores y apostamos

en garantizar la autonomía de las mismas de manera que el enfoque de la atención al paciente esté más centrada en sus capacidades y menos en la enfermedad

usted nos acusa de no ser claros en la enmienda yo creo que somos respetuosos con el trabajo de evaluación que está realizando el departamento

decía al final de su intervención hoy tendrá que cumplirse todos sabemos que

que el departamento de salud cumple en esto y en lo demás la cuestión

sino el cómo y para cumplir bien en el cómo es necesaria esa evaluación eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

llama la atención debatir en este momento sobre la incorporación de especialistas geriatras a la cartera de servicios de osakidetza cuando hace

aprobó instar al gobierno vasco a trabajar en esa línea de ahí que el debate señor barrio debería centrarse en qué se puede hacer con un ejecutivo que no atiende lo dispuesto en esta cámara y que la utiliza poco menos que como canal de propaganda

el debate sobre la incorporación de geriatría y gerontología como especialidades sanitarias

hay debate entre los propios profesionales y también hay alternativas para prestar dicha atención a través de otros profesionales generalmente de atención primaria

pero hay un dato significativo y es que la comunidad autónoma vasca es de las pocas de españa que sigue sin incorporar

no sé si es una nueva muestra de la especificidad vasca

una mejor atención a las personas mayores vamos a votar a favor de la moción del partido popular

a la nada todo lo que aquí se apruebe por otro lado creo que a estas alturas no es necesaria una experiencia piloto en un hospital vasco porque se trata de ponerse manos de seguir el camino por el que han optado el resto de comunidades autónomas

una moción sobre gerontología pasa por el parlamento vasco e intenta colarnos el debate sobre la incorporación de otras especialidades

interesante pero que no es el mismo para fisioterapia odontología y oftalmología que deberían de llegar a esta cámara como debates monográficos

señora gonzález y esperamos que traigan estas especialidades a futuros plenos

y sobre todo mejor estarán nuestros mayores por lo cual en eso también le aplaudimos en resumidas cuentas geriatría en la cartera

sí a debatir la incorporación de otras especialidades también no a pruebas pilotos consideramos que no es necesario y no a las cortinas de humo de este gobierno
embebido en sí mismo e inoperante muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

gracias presidenta bien yo he sacado una cosa bastante positiva de este debate

en la atención a los mayores y eso pasa esencialmente por los geriatras los gerontólogos y la enfermería

estudiar el marco en el que se integren con otras modalidades con otras fórmulas organizativas pero la cuestión pasa por lo esencial que es el especialista que es el que va a tratar con las personas mayores sus problemas y yo creo que eso es bueno es decir yo creo que eso sale

algunas cuestiones o sea que yo lo que pido es que esto sea inminente

la estrategia de crónicos yo fui testigo la apoye era presidente de la comisión de sanidad en aquel momento en el parlamento vasco

a esa estrategia y yo vi precisamente esa estrategia como un paso también o una puerta abierta

integración gerontológica en el sistema sanitario igual si hubiese durado un poco más el señor bengoa un poco más en aquella legislatura igual

ahí está y eso fue hace tiempo ya hace tiempo pero bueno vamos a dar pasos en ese sentido señor aiartza

sí y el escenario además de la pandemia ha añadido argumentos al escenario del envejecimiento y de las necesidades de cuidado o sea que en ese sentido sí que es clásica pero es muy moderna o muy reciente en relación

cómo hemos incrementado los argumentos en relación con este tema en este año de pandemia y me dice o me insta

deje evaluar señor aiartza lo llevo haciendo doce años es decir

desde que se aprobó en dos mil nueve la iniciativa que lo llevo haciendo desde entonces porque luego además los consejeros han hablado

para integrar las nuevas especialidades o sea que yo claro que dejo hacer y le voy a seguir dejando hacer porque claro no van a aprobar mi iniciativa

esa reflexión está hecha y ustedes saben que está hecho

barajaba la consejera en relación con la necesidad o sea que

esa reflexión ya se ha hecho tendría que haber conclusiones de momento no las hay pero las conclusiones se llaman incorporar a esas figuras que es el elemento clave de la atención a las personas mayores eso es lo fundamental la evaluación en relación con estas cuestiones la valoración sobre geriatría ya está hecha son necesarios los geriatras y las enfermeras geriátricas

en nuestra sanidad pública tienen funciones muy importantes que cumplir que se han puesto además de manifiesto en la atención primaria

hospitalaria en otros ámbitos en el país vasco además hay muy buenos profesionales de la geriatría que se emplean

en la sanidad privada o en los servicios sociales

sanidades de españa y del mundo y desde luego que en ese sentido es necesario es muy probable además además por lógico

especialistas geriatras y gerontólogos en la red pública sanitaria de cualquier parte la incidencia de la covid diecinueve en la población mayor es muy probable que hubiera sido más reducida

mejor gestionada es un elemento de reflexión ese también por eso yo creo que debieran de aprobar mi enmienda es una enmienda clara va a coadyuvar al elemento de reflexión

va a tener como fin la incorporación de los geriatras en el sistema sanitario muchas gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos ezker anitza

por el apoyo a la incorporación de otras especialidades también

yo quiero decirle al señor carmelo barrio que me parece muy pertinente que las personas que llegamos aquí ver que hay gente que lleva doce años peleando por temas tan concretos que los han traído una y otra vez al parlamento

casi de grado pero merece nuestro apoyo es una iniciativa muy concreta muy clara lo de la evaluación es que

una y otra vez una y otra vez una y otra vez nos encontramos con esta respuesta del gobierno estamos evaluando desde hace doce años que se aprobó por mayoría en esta cámara jo y tenemos que estar dejando pasar tiempo y tiempo y llegar una pandemia

y ver lo que está pasando con las citas presenciales y ver a un movimiento de pensionistas que sale todos los lunes a la calle los problemas que se encuentran los problemas que se encuentran en la sanidad no podemos dejar pasar ni un minuto más evaluando

se tienen que poner manos a la obra y desde mi grupo parlamentario les décimos

pero otras muchas figuras que se están demandando en la sanidad pública y que no se están reforzando y que no llegan

pero es que cualquiera de nuestras mayores que tenemos cerca sabemos que si tienen que ir a la podóloga se lo pagan que sí tienen problemas con la boca se lo pagan que en osakidetza hay

en este tema vamos a votar a favor de la iniciativa que presenta el partido popular estamos a favor también

le va a salir una entrevista de la única geriatra que hay en la red pública y que dice

es una inercia del gobierno o sea eso es una apuesta política es una apuesta política por que no estén así de claro estamos a favor

quiero confiar que esa evaluación sea rápida se materialice rápida

que dentro de poco sean muchas más geriatras

y vamos a estar pendientes porque el señor carmelo barrio no se merece otros doce años de espera de una evaluación para que se incorporen pediatras eskerrik asko

eskerrik asko gauza asko esan dira y no se merece carmelo barrio doce años de espera pero sobre todo no se lo merece la ciudadanía

eta hala deitu diozue ere el decreto de gobernanza sociosanitaria bueno que no va a desplegar servicios no lo que va a hacer según lo que

coordinar los servicios ya existentes pues bueno

eta ihesean en el considerar oportuno valorar la posibilidad en la evaluación del plan de dos mil trece dos mil veinte que estamos ya en dos mil veintiuno ojalá venga pronto y veamos a ver ahí qué se ha cumplido qué no non dagoen betetze maila eta ikusiko dugu

enmienda igual el parlamento insta al departamento de salud a que considere la posibilidad de ir incorporando especialistas considerar la posibilidad igual puede

facilitar las condiciones necesarias para poder desarrollar organizar

y desarrollar plenamente el espacio sociosanitario firmado por

pues nada tres puntos tres compromisos

parece que hace más de una década ya teníais claro que había que incorporar especialistas en geriatría gerontología a la red de osakidetza pero bueno hoy vuestra propuesta es

ez dakit es que eta argiak eta zintzoak izan podéis ser transparentes y decirle a la ciudadanía si el día de mañana va a tener acceso a un servicio público de gerontología de geriatría en osakidetza sí o no bai edo ez

si van a poder trabajar en osakidetza como geriatras y gerontólogas y como enfermeras especializadas sí o no bai

para tratar de forma integral a las personas de mayor edad esan dugu son un colectivo

de repente en estas segundas intervenciones de una manera alucinante o sea a mí me está pareciendo alucinante les ha sacado aquí les ha faltado sacar no sé la culpabilidad de este gobierno en la segunda guerra mundial

porque de verdad que estoy alucinado con estas segundas intervenciones

sobre servicios sociales pone a euskadi en la nota de excelente de excelente que subimos posición a excelente

haría a la ciudadanía que nos ha puesto aquí a todos y cada uno de nosotros

pero hombre venir aquí a decir que todo está fatal que no se hace nada cuando todos los indicadores demuestran absolutamente todo lo contrario pues es igual de reprobable que si yo hiciera lo contrario y eso se lo tengo que decir

es que está todo para no tocar para no tocar y con la pandemia bueno

que no se está haciendo nada bien es igual de ridículo igual de ridículo

además cuestiones que sinceramente me parece un poquito hasta perverso no decir

hubiera habido menos víctimas con el covid hombre hay comunidades autónomas donde hay gerontólogos y las víctimas han estado por encima por encima las víctimas mortales

desgraciadamente ha habido muchísimas víctimas mortales yo creo que la gran falla que se ha dado en toda europa y es así

pongamos encima de la mesa los datos no lo primero que se nos ocurre no lo primero que nos viene bien

señora garde yo le voy a ser absolutamente claro mire yo quiero que esta legislatura sea la legislatura en la que se avance en la atención integral integral

en el ámbito sanitario y esa es la apuesta eso es lo que está recogido en el acuerdo de gobierno suscrito entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco es lo que está recogido en las directrices del departamento en las líneas de actuación

hacer y es así y el señor bengoa en el año dos mil nueve porque es verdad que esto lleva señor

doce años usted lleva planteando esta cuestión doce años

dijo esa frase que yo hoy le he leído y es que

a uno u otro especialista esto requiere de actuaciones integrales y ese es el objetivo y en eso es en lo que estamos claro y está muy bien venir aquí

desde la oposición al menos sea una crítica en base a hechos es lo único que les pido no les pido que estén de acuerdo pero sí les pido

no suelten lo más grande que se ocurre en cada momento para intentar

que por lo menos se basen en datos nada más y gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro yo creo que el señor barrio sí se lo merece se lo merece

sí se lo merece porque es un reconocimiento no en esta cuestión no en otras cuestiones seguramente no en todas las cuestiones pero eso nos recuerda

cuestiones que usted nos trae y que nos hacen también en ese sentido rememorar pero actualizarnos

del señor rico hemos podido contemplar de nuevo

sectorializada de la teoría del caos esto es un caos esto es un caos y hacía referencia el señor rico a datos

un momento en esto de las teorías del caos

una comparecencia de no hace mucho tiempo hace poco le he vuelto a ver que ha hecho unas declaraciones en la misma línea

por la defensa de la sanidad pública marciano y me tiene que disculpar marciano porque

se me ha olvidado su apellido y estábamos en aquella comisión en su día

transparencia estábamos en la teoría del caos

y cuando marciano puso la primera transparencia se acabó la teoría del caos cuando venía a solicitud de la portavoz que era la portavoz de la teoría del caos también con lo cual realmente creo que a mi juicio como ha dicho el señor rico

algún ejemplo señora gonzález como el ejemplo de los pensionistas no es el más apropiado a mi juicio

las valoraciones que tenemos de un gobierno de otro gobierno

ejemplo que utilice ese ejemplo si vamos

a algunas concretas de las reclamaciones para las que los pensionistas se unieron y siguen unidos y reclamaciones que siguen haciendo

no me parece un ejemplo adecuado sencillamente eso con lo cual quiero

del debate el señor barrio decía se constata la necesidad de esto

se constata que tenemos la necesidad bien puede haber indicadores nosotros

en nuestra enmienda también apostamos porque el departamento de salud vaya por esa línea

necesitamos un elemento técnico y ese elemento técnico es la valoración la evaluación y aquí se ha utilizado de forma perversa

y valoraciones y valoraciones no hay un plan un plan el plan de salud dos mil trece dos mil veinte

ahora no planes y planes y planes se valora ahora lo que hemos dicho desde el principio es esperemos a la valoración

que es nuestro plan el plan dos mil trece dos mil veinte que incluye esa línea estratégica específica sobre envejecimiento
cronicidad y dependencia de acuerdo eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna mistoak

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos hoy venimos a pedir una cosa muy sencilla que se respete la ley ni más ni menos en concreto

por la que se regula el uso de la bandera española y el de otras banderas y enseñas el respeto a la ley es fundamental es un fundamento básico de cualquier sociedad

esta iniciativa no es nueva se ha discutido en otras ocasiones y desde vox queremos entrar en este debate desde una perspectiva similar a las que nos han precedido

la ley de defender la igualdad de todos los españoles a su vez me quiero adelantar a los comentarios acerca de si nos adueñamos o no de la bandera nacional en vox solo pedimos que se respete la bandera que nos representa a todos que nos iguala ante la ley una bandera la nacional que no le pertenece a nadie sino que simboliza

ideología y raza es interesante destacar cómo consiguen cambiar la percepción de la sociedad y hacer el comentario facilón de ya viene la derecha con sus banderitas cuando lo cierto es que son ustedes los que se gastan catorce mil euros en una ikurriña del tamaño de la catedral

ni a los autónomos euros que se destinan en una bandera gigante

a todos divide y vencerás nadie mejor que ustedes aplica esta máxima recuerdo una interpelación al lehendakari ibarretxe sobre este mismo tema él decía que al pnv no le preocupaban las banderas y además acusada en tono jocoso

que el objetivo del pp era pegar al nacionalismo vasco con el mástil de la bandera española sin embargo a los hechos me remito los que día tras día dan la matraca con las banderas son ustedes

son ustedes los románticos exaltados los verdaderos fanáticos y los peligrosos y no vox cuyo historial

el hecho la realidad más allá de la carga teórica que ustedes de manera perniciosa le aplican

claro y conciso lo pueden ver en la constitución del setenta y ocho esa que vilmente este parlamento se encarga de usar a demanda y si les interesa gritan viva la constitución así lo hemos estado viendo estos días con la cuestión de la transferencia de prisiones no tardan ni medio segundo en convertirse en adalides

pero cuando hablamos de soberanía de igualdad ante la ley o igualdad de oportunidades ustedes la desprecian por completo e incluso aprovechan para insultarnos y llamarnos

no se puede trabajar es un imposible no son de fiar son sectarios y están absolutamente viciados en cualquier caso hay motivos para denunciar hoy que se incumple la ley pues claro por eso hemos traído esta iniciativa para no ser excesivamente cargante me ceñiré a los últimos tiempos y destacaré los puntos claves de la legislación a la que hoy nos atenemos

los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas estas

pero hay algo más específico la ley que hoy nos trae aquí y que es además muy clara les haré una breve selección de los puntos que ustedes se saltan artículo tercero

institucional autonómica provincial o insular y municipal del estado

la bandera de españa así como el escudo de españa se colocará en los locales de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares en las residencias de sus jefes y en su caso en sus medios de transporte oficial artículo punto cuatro

esta se utilizará juntamente con la bandera de españa en todos los edificios públicos del ámbito territorial de aquella en los términos de lo dispuesto en el artículo sexto de la presente ley y les paso a leer el artículo sexto para que vean lo interesante de lo que les voy a enseñar en breve

cuando se utilice la bandera de españa ocupará siempre un lugar destacado visible y de honor punto dos

no podrán tener mayor tamaño se entenderá como lugar preeminente y de máximo honor cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar la posición central

o la izquierda del observador les invito después de decirles todo esto a acudir al portal de transparencia irekia allí podrán ver que resulta casi milagroso ver una bandera española en cualquier acto oficial donde sí que está siempre

sírvase como ejemplo esta reunión interterritorial telemática se puede ver que todos los presidentes autonómicos están con la bandera nacional y con la bandera propia si la tienen menos el señor urkullu aquí solamente vemos la ikurriña por qué

tenemos también una reunión de hace pocos meses febrero aquí la tenemos es una reunión

laya la bandera de españa tampoco aparece por ningún lugar

podríamos seguir así hasta la noche pero creo que ha quedado meridianamente claro aunque tampoco podemos dejar de mencionar el encuentro con el embajador de emiratos árabes que fue recientemente en la que tampoco estaba por ningún lado la bandera de españa eso sí salvo en un lugar en la mascarilla del embajador

sabemos que buscarán de hecho todas las triquiñuelas a su disposición para decir que cumplen con la ley pero no les dejaremos seguiremos dando la batalla en resumidas cuentas hoy retomamos el trabajo que el partido popular

en los últimos tiempos ha sido el grupo mixto vía upyd y vox quien recupera esta cuestión

estar juntos e ir de la mano en la defensa de españa teniendo claro quiénes somos los serios y los que cumplimos con lo que dicen también les hemos ofrecido visto el historial del pse y de la propia enmienda que han hecho a nuestro punto firmar una transaccional cabe decir que la generosidad de vox en este punto es total pues se trata de una enmienda que además le debe de sonar mucho al señor txarli prieto ya que es calcada

cuáles son los motivos para no firmar ni tan siquiera comunicarse con vox

les puede el odio a vox frente al respeto a la bandera del país que ustedes gobiernan

cuánto vale la traición de españa un puesto de vicelehendakari ustedes son el gobierno de españa también el gobierno de esta autonomía con independencia de lo que ustedes hagan y de las contradicciones que supone además el no firmar nuestra iniciativa les anuncio que nosotros sí que apoyaremos la suya su enmienda

no serán en forma de iniciativa parlamentaria sino que serán los jueces los que tengan que ponerse a trabajar muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

egun on guztioi ojo que la salvaguarda del espíritu patrio no solo nos vigila sino que además nos amenaza mire señora martínez esta cuestión podría estar liquidada en aproximadamente medio minuto primero porque es un debate ficticio

y porque el gobierno vasco desde luego cumple estrictamente con lo que dice la ley punto

porque desde luego si tienen indicio de que dicha ley se incumple lo que deben hacer es elevar

ningún tipo de debate que creo que no nos aporta absolutamente nada es una pena desde luego que es una pena

iniciativas que realmente sean productivas o cuando menos que susciten el más mínimo interés en la sociedad

nosotros al respecto poco o nada tenemos que decir pero desde luego a mí no me tendrá perdiendo el tiempo de irekia a ver si tal o cual departamento ha cumplido o no con los que establece la normativa sobre la correcta colocación de banderas en cada uno de sus actos a mí me tendrá

la piel para superar esta pandemia me tendrá en el apoyo a los trabajadores públicos de la sanidad de la educación de lanbide que en una situación muy complicada están tirando adelante para que esos servicios no se resientan me tendrá la búsqueda de soluciones para nuestra industria para los pequeños comerciantes

hoy mismo en esta cámara se han tratado algunas de esas cuestiones y a mí me encontrará en esos debates también por supuesto en el control y la crítica al gobierno

antes de que ustedes entrasen en política creo que hemos perdido ya suficiente tiempo y energía con las guerras de la bandera y ese cupo afortunadamente un servidor ya lo tiene cubierto señora martínez mire a usted y a mí nos separan muchas cosas diría que afortunadamente y especialmente en lo

y esta iniciativa creo que lo demuestra y es la propia concepción que tienen ustedes

parece que se limita exclusivamente a la exhibición de la bandera ojo y si le dejan le valdría únicamente con el mástil para

es algo mucho más importante mire hace unos días se conocía la noticia de que cada estadounidense ingresado por el coronavirus ha tenido

y leíamos historias tremendas en esa noticia como la de un hombre

por el coronavirus tiene que enfrentarse a una reclamación

en hablar en esos términos es algo o significa algo en el que eso precisamente no ocurre es un lugar en el que se atiende al que lo necesita en el que no se deja a nadie atrás si por algo quiero trabajar

por avanzar en ese estado social y de derecho que nos garantiza la libertad y la igualdad entre diferentes

sobre banderas tengo plena confianza en los y las responsables de protocolo para que las coloquen

gracias presidenta de nuevo lehendakari consejeros señorías bien brevemente la señora martínez

nodebería ser objeto de crítica no pedir en el parlamento que se cumpla la ley pues

a votar a favor de su iniciativa si la obligación del gobierno vasco es cumplir la ley la

en este caso tenemos que referirnos a la ley

pues que lo cumpla si el grupo proponente ha identificado incumplimientos en relación con el cumplimiento de la ley

tampoco está mal que lo traiga al parlamento debatimos sobre eso

ha acusado al gobierno de que no se ponen las banderas cuando hay que ponerlas

o sea que tenemos que hablar de eso y tenemos

y es bueno además que cuando se detecta un incumplimiento de una ley desde luego se llame la atención a veces podemos interpretar lo que es

entonces la obligación del gobierno es cumplir la ley por eso nosotros vamos es decir

a favor del cumplimiento de las leyes incluso de las que no nos gustan

representen a europa a españa a la comunidad autónoma pues que se pongan y ya está porque lo dice la ley y porque nos gusta

también otras figuras políticas podían estar atentas no sé el delegado del gobierno los subdelegados del gobierno

a esta práctica que se hace en las instituciones públicas cuando se identifican incumplimientos así que yo creo que también

también sería bueno que las autoridades competentes también lo pudiesen identificar y actuar en consecuencia nosotros

con la enmienda que ha presentado el grupo socialista el parlamento vasco muestra su compromiso con el cumplimiento íntegro del ordenamiento jurídico y en concreto de la ley treinta y nueve barra ochenta y uno es el fundamento

de mi intervención yo quiero decir también y que recordar que mi grupo

también identificó incumplimientos en su momento los puso de manifiesto y se habló sobre eso en esta cámara y también

desde la delegación del gobierno desde las subdelegaciones cuando gobernábamos en españa y desde luego la actuación tuvo sus frutos

señor andueza para empezar le diré que traemos al debate aquello que consideramos oportuno al igual que hace usted y no le ponemos pegas eso para empezar

señor andueza usted es demagogia pura y dura todo lo que traemos a este parlamento le parece irrelevante es algo que dábamos por hecho pero vamos

respecto a su postura francamente qué ha cambiado en los últimos años para que no puedan firmar lo que sí firmaron hace nueve años no consigo entenderlo tanta razón tienen los de la vieja guardia del psoe que reniegan de sánchez

la transacción propuesta es un calco de la que se firmó con upyd y pp qué es lo que ha cambiado ahora señor prieto lleva muchos años en este parlamento y no conseguimos sinceramente ver qué es lo que ocurre

al señor prieto por supuesto lo tengo por un hombre inteligente y me cuesta entender su posición desde que entró vox en este parlamento han tenido dos momentos de contradicción notables los dos según usted no tienen relevancia el primero fue respecto a los ongi etorris se acuerda señor andueza usted votó no se acuerda tampoco era irrelevante para usted verdad el otro es el de hoy donde dejan de firmar lo ya que firmaron incongruencia total la suya y demagogia por supuesto lo puedo decir más alto pero no más claro

se recoge en estas tres franjas de la rojigualda y usted lo sabe en esa bandera estamos todos vuelvo a repetir todos

asegurando la igualdad ante la ley y el principio de igualdad de oportunidades le pido un gesto mínimo de patriotismo votar sí para que se cumpla la ley no he dicho nada más

espero que no cometan el error histórico ya en ustedes de votar no pues cometerían un acto de traición y entenderán que siguiendo la máxima del cónsul escipión

siempre referente para este orador veo que tiene usted grandes y buenas admiradores en esta tribuna le felicito por ello

no ocurriría absolutamente nada veo que prefiere la suya que por otra parte también es lógico y es perfectamente respetable

aquellas cuestiones que considere oportuno contra eso en mi primera intervención ya le he dicho nada que objetar otra cosa es lo que pueda opinar de la calidad del calado del interés que pueda suscitar esa iniciativa en la sociedad vasca en la que

a este país es instrumentalizar sus símbolos es el peor

muchas veces lo único que puede provocar es precisamente que alimenten el extremo contrario al suyo eso es lo único que puede provocar su obsesión por patrimonializar los

es evidente y aunque haya dicho que no me parece

lo han hecho muchas veces yo me acuerdo cuando algún otro partido de la derecha

en contra del gobierno de zapatero por su política antiterrorista lo primero que hacían era sacar la bandera de españa no sé yo muy bien qué relación tenía una cosa con otra pero el caso es que la utilizaban cualquier excusa es buena para agitar la bandera española y como le he dicho en mi primera intervención oiga

al enemigo porque creo que para ustedes muchas veces no hay adversarios políticos sino

ver una noticia en un medio de comunicación en el que decía la polémica propuesta de vox en murcia poner el himno de españa en los colegios cada mañana

y una foto del rey yo diría que están perdiendo facultades

ustedes la salvaguarda del espíritu nacional y del espíritu del movimiento

si ustedes dijeran que quieren una bandera de españa constitucional por supuesto y la figura del rey hombre de ustedes esperábamos mucho más

están perdiendo ustedes muchas facultades en cualquier caso a mí sí me resulta bastante curioso que ustedes

se declaren constitucionalistas cómo un partido puede ser constitucionalista cuando está en contra de la igualdad cómo un partido puede considerarse constitucionalista

lo que es una crisis humanitaria cómo puede declararse constitucionalista un partido que está

del estado de las autonomías ustedes tienen de constitucionalistas lo que yo les diga ustedes lo que lamentan es que no vivamos en un país

y en el que todo el mundo no sea igual que ustedes pero afortunadamente este país es plural es diverso y me atrevería a decir que es inteligente para no caer en este tipo de provocaciones

y desde luego salir de una situación muy delicada que desde luego en las banderas no tiene ningún tipo de referente ni de interés eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

yo por centrar el tema en el objeto de la cuestión que quiero decir desde aquí es pedirle al gobierno que si

de banderas que lo corrija porque es posible que se le haya pasado en algún acto y entonces ha habido un incumplimiento sin querer pero si es queriendo ya será peor así que si hay

y por otro lado yo quiero decir que utilizar los símbolos es normal y además

si lo dice la ley y utilizar la bandera de españa cada uno libremente desde luego señor andueza no es instrumentalizarlo muchas gracias

la iniciativa que se había planteado o presentado inicialmente sobre

las ayudas y subvenciones a empresas que se encuentran

recibió dos enmiendas a la totalidad una de nuestro grupo que sobre todo lo que hacía era incidir en dos elementos a los que me referiré a continuación y luego recibió una enmienda a la totalidad de los dos grupos que sustentan al gobierno con el texto más o menos

a un acuerdo de última hora en el que cambian bastante radicalmente la redacción de bastantes cosas en el debate en la presentación de la iniciativa ahora la verdad es que no me he enterado muy bien de algunas cuestiones

me centraré en la iniciativa que se va a votar ahora que

que pueden ser positivos efectivamente pero que también tiene otros elementos que en fin

tienen razón los grupos del gobierno son cosas que ya se estaban haciendo por lo menos es lo que nos suelen decir

el primer punto bueno esto viene para empezar aunque

en la introducción en la presentación y defensa inicial de esta iniciativa esto se trata de un paquete de medidas aprobadas por parte del gobierno central el gobierno de la nación ahora se llama el gobierno de españa a través de un decreto ley

y que aprueba un paquete de medidas de doce mil millónes de euros de

que son ayudas directas a autónomos y empresas para gastos fijos y deuda que son las que van a gestionar las comunidades autónomas la nuestra además tiene una especialidad también interna como ya se sabe por el tema de diputaciones forales etcétera y luego tenemos

una línea para la reestructuración de deuda financiera y mil millónes en un fondo de recapitalización

se han repartido que es el fondo global como se sabe

utilizando unos criterios de renta desempleo índices de paro juvenil etcétera con lo cual euskadi lo que va a recibir es el tres coma once por ciento de estos fondos concretamente doscientos dieciocho millónes de euros euskadi

y hombre el tres coma once por ciento de los recursos pues bueno suena poco no es proporcional en todo caso y el gobierno vasco entiendo que está intentando atraer fondos

concretamente se ha solicitado el ocho coma dos por ciento de los fondos next generation la propuesta que finalmente

lo que inicialmente habían propuesto cada uno de ellos introduciendo además una serie de elementos adicionales que antes no estaban

de lo que se habla es de que el parlamento se entiende que es el parlamento vasco inste al gobierno vasco a incluir en la futura convocatoria pues además de las actividades económicas que ya estaban contempladas en el decreto ley pues introducir nuevas actividades económicas susceptibles de recibir ayudas eso el gobierno tendrá que tener tendrá que ser muy prudente la forma de gestionar esto evidentemente porque tiene que respetar lógicamente el decreto ley no es cierto que ya algunos grupos en el congreso han presentado pnl precisamente para que se modifique el decreto ley

ampliando el número de sectores ninguno de los grupos proponentes por cierto

el grupo popular dos iniciativas del grupo popular y una iniciativa del grupo vox pero de los grupos proponentes no hay ninguna en el congreso curiosamente que en este caso a mí cuando presentó iniciativas en las que se suele instar o se insta a veces al gobierno central

me censuran en ese sentido que el parlamento vasco que se tiene que centrar en el caso del país vasco y tal hombre pues aquí yo creo que

yo creo que también tienen grupos todos ustedes en el congreso de los diputados es el argumento que me darían habitualmente

se podría aprobar por decreto ley que es la forma que tiene este gobierno de legislar y de gobernar últimamente primero legisla la ley

si se convalida efectivamente y luego si se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia el punto dos

dice aportar recursos del presupuesto propio vigente se entiende desde el gobierno vasco

evidentemente aquí habría que un poco definir qué partidas con qué partidas

se está contando sí evidentemente hay que aportar y nosotros estamos de acuerdo en eso

a los sectores más afectados pero en fin efectivamente es bueno que se aporten recursos echo de menos que se haya especificado en alguna medida

vamos a echar mano para esto en tercer lugar el tercer punto este es el típico que si lo propongo yo me dirían no señor gordillo si esto ya se está haciendo

lo que tiene que ser es por supuesto lo más sencilla para el administrado como se suele decir en derecho para la persona que solicita la ayuda tenemos ejemplos ahora en la diputación foral de bizkaia no me meteré ahí

al administrado y facilitarle la vida a las empresas y a las personas

había contratado cuarenta y tres personas precisamente para eso con lo cual en el punto tres yo no sé si al grupo proponente le han hecho un poco trampillas porque ahí hay una cosa que en principio

está bien que se establezca que efectivamente pues hay que dotar de medios humanos y materiales lo que pasa es que esto tiene que ver con el último punto que me gustaría tocar

el punto cuatro que es garantizar la simplificación del procedimiento administrativo evidentemente para mí este es

la simplificación del procedimiento administrativo sobre todo tendría que venir no solamente por el punto cinco que aparece también en la finalmente en el texto de transacción de asegurar que las aplicaciones y sistemas informáticos garantizan el control de tiempos plazos

que efectivamente no hubiera que tampoco aportar documentos que ya habían sido

se puede entender que lo dice en el punto cuatro lo único es que

para el ciudadano solo hay una administración es decir nosotros al final hay distintos niveles de la administración

lo que realmente se echa de menos y ya voy terminando

en esta iniciativa sobre todo el fomentar la coordinación entre administraciones eso es lo que nosotros proponíamos en nuestra enmienda a la totalidad favorecer la coordinación entre administraciones porque es verdad que puede haber administraciones que ya tengan documentación que ya poseen documentación vamos a ver en el caso nuestro en euskadi es que las administraciones tienen prácticamente toda la información relevante porque normalmente la que le suele faltar a las administraciones es la fiscal

entre el ayuntamiento la diputación foral de turno y luego el gobierno vasco lo cierto es que ya tienen prácticamente todos o casi todos los datos necesarios para

y no figura eso de la coordinación entre administraciones en la iniciativa no figura de hecho

eso es una cosa que en nuestra opinión falta y en segundo lugar también faltaría

una evaluación de las medidas que exista una evaluación de las medidas porque sobre todo en este proceso se está aprendiendo que a veces por tradiciones administrativas por distintas cuestiones pues no se habían planteado a lo mejor algunas posibles situaciones que se han producido con prórrogas de los erte los estamos viendo luego con temas fiscales etcétera

evaluaciones de las medidas que se van adoptando para poder corregirlas no obstante lo cual solicitaremos a los proponentes votar por puntos y en algún punto

quiero empezar mi intervención recordando el programa de gobierno concretamente su eje cuatro de autogobierno y dentro del mismo el área de actuación de gestión pública transparente y responsable porque es precisamente en este marco donde se recogen los compromisos de en la consecución de una administración más cercana sencilla y eficiente que evite duplicidades impulsar una administración más abierta y transparente que rinda cuentas a tiempo real

y es que la consecución de estos compromisos es clave para dar cumplimiento a los aspectos de fondo que plantea

eh bildu y la enmienda transaccional a la que hemos llegado a acuerdo

aprobar la ley del sector público que incluya mecanismos de colaboración y coordinación que evite posibles duplicidades entre los diferentes niveles institucionales

impulsando la digitalización y con un enfoque de simplificación y proactividad hacia la ciudadanía impulsar una base sólida de gobernanza de datos que permita entornos confiables y seguros para el intercambio y la reutilización de datos

culminando la interoperabilidad entre administraciones y con el sector privado creando

unificada y aprobar la ley de transparencia y participación ciudadana que garantice la transparencia de la administración ante la ciudadanía estimule su participación

de cuentas en tiempo real es fundamental impulsar la evaluación de las políticas públicas y los instrumentos que las desarrollan

los datos de las ayudas que se han desplegado desde el gobierno vasco para mitigar lo más posible los efectos de la pandemia y ayudar a la recuperación económica se han articulado ayudas directas a través de todos los departamentos del gobierno salud educación vivienda políticas sociales empleo desarrollo económico hacienda

y de más de quinientos millónes de euros para dos mil veintiuno a lo que hay que sumar las líneas de avales

en total las ayudas directas y gastos extraordinarios presupuestados de las instituciones vascas a la crisis sanitaria provocada por la covid asciende a día de hoy en términos globales a dos mil ciento noventa millónes de euros

corresponden al gobierno hablamos de esfuerzos y medidas extraordinarias para dar respuesta a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus

y efectivamente se están ejecutando muchas líneas de subvenciones para el sostenimiento del empleo de los autónomos y de los sectores que se han visto más afectados

el turismo y la cultura entre otros los sectores del turismo comercio y hostelería han contado con unas ayudas directas hasta la fecha dentro del plan de resistencia

estas ayudas han supuesto un esfuerzo humano reforzando el equipo técnico del departamento

habilitando al personal del equipamiento tecnológico necesario y un esfuerzo técnico por parte de ejie implementando un sistema informático que soporte el elevado número de solicitudes registradas y facilite la tramitación y gestión de las mismas por ello coincidimos en que la gestión de las nuevas ayudas directas plantea grandes desafíos por la magnitud de las mismas

volumen de solicitudes de las mismas personal necesario para tramitar dichas ayudas espacio físico para instalarse los equipos informáticos y los aplicativos informáticos necesarios esta situación de pandemia sin precedentes nos ha hecho priorizar y atender necesidades y detectar áreas de mejora

de ayudas nuevas actividades económicas susceptibles de recibir ayudas garantizar la simplificación del procedimiento administrativo correspondiente a la gestión

y asegurar que las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la gestión de las convocatorias garanticen el control de los tiempos y de los plazos por ello

ya que en nuestra opinión recoge el espíritu y el fondo de las cuestiones que planteaba su iniciativa original y espero que pueda sumarse el resto de grupos no obstante

y no solo con su grupo sino también con el grupo vasco popular ciudadanos

y que agradezco que lo podamos debatir en otro momento para poder sacar adelante esta iniciativa pero sí me gustaría aprovechar para exponer brevemente nuestra opinión al respecto esta exigencia encuentra su amparo legal en lo que se refiere a la normativa del estado en la ley treinta y ocho barra dos mil tres

el artículo trece de dicha ley dice no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley

el no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

que por naturaleza de las subvenciones se exceptúe de su normativa reguladora y es que la ley general de subvenciones del año dos mil tres en el artículo trece punto dos

la administración también las administraciones autonómicas y locales

siempre que esté sujeta a una justificación excepcional por la naturaleza de las convocatorias

galicia andalucía o extremadura y también algunos

donde después de estudiar de forma específica la complicada situación que están pasando pymes y autónomos de sectores vinculados a la hostelería el comercio el turismo la cultura han lanzado convocatorias de ayudas empresariales recogiendo esta excepcionalidad acreditada por lo tanto se puede hacer

y es que son precisamente ellas las convocantes de las ayudas y por tanto pueden regular su propia normativa no es necesario que el gobierno interfiera en sus competencias además cabe recordar que desde el ministerio de hacienda y las diputaciones forales se han adoptado acuerdos sobre ampliación y moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones

moratorias por la devolución de prestamos hipotecarios y por el pago de alquiler cuando se concede una de estas ampliaciones moratorias o aplazamientos de deudas

mediante el certificado que le emite la seguridad social y la administración tributaria

y subvenciones que se publiquen por tanto la exoneración no puede tener de ninguna forma un carácter genérico sino que tiene que acreditarse y motivarse de manera muy clara

porque si no estaríamos generando discriminación al no respetar el principio de equidad distributiva dado que la recaudación de los tributos beneficia al conjunto de la ciudadanía

progresivo y suficiente que garantice los principios de confianza estabilidad y seguridad jurídica

así como el óptimo equilibrio entre los ingresos y gastos públicos combinando el rigor económico y presupuestario con la garantía de los servicios públicos esenciales

legebiltzarkideok eguerdi on hoy solamente podemos hablar de la gestión de los fondos contemplados por el real decreto cinco barra

y hablar en lo que toca a este gobierno desde el punto de vista fundamentalmente

administrativo se trata de un real decreto en el que el papel de las administraciones autonómicas queda circunscrito al de la gestión administrativa

hablamos de gestionar doscientos dieciocho millónes de euros para establecer medidas adicionales de refuerzo de la solvencia de aquellas empresas

empresas no financieras y autónomos con fuertes caídas en sus ingresos debido a la reducción de su actividad como consecuencia del alargamiento de la

son ayudas finalistas que deben aplicarse a la satisfacción de pagos a proveedores y otros acreedores y además el decreto establece claramente el orden quién va a cobrar primero

cuantías y plazos y pone claramente

de dos mil veintiuno qué nos queda por hacer

de los expedientes de ayudas y su control cuál es la previsión que tiene el gobierno vasco en este sentido

algunas ya han sido citadas en primer lugar proceder a la contratación de personal para gestionar dichos fondos habiendo previsto lanzar la correspondiente convocatoria el próximo mes de junio

estamos hablando como ya se ha dicho de la contratación de cuarenta y tres técnicos por un periodo de un año ampliable a otro

gestión y resolución de las solicitudes del abono de las ayudas de los controles previos al pago y del seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas

no va a ser nada desdeñable y evidentemente

en la enmienda transaccional en primer lugar aumentamos los sectores que no estando incluidos en la propuesta inicial del decreto estimamos que también deben ser objeto de ayuda complementando completando mejor dicho algunas carencias que a nuestro entender y como ya lo hicimos en el congreso de los diputados el real decreto puede contener en segundo lugar el gobierno vasco

en tercer lugar apostamos si fuera necesario por reforzar la plantilla destinada a la gestión de las ayudas si se observa que con las cuarenta y tres personas contratadas no se alcanza el ritmo de tramitación adecuado se contratarían más técnicos en cuarto lugar se hace una apuesta clara por simplificar

administrativos y para finalizar apostamos por el empleo de herramientas de gestión que aseguren una correcta

egokia lortzeko beharrezkoak diren baliabide guztiak bideratzeko en definitiva vamos en parte más allá de lo establecido por el propio real decreto

en este acuerdo estamos dejando claro el compromiso de los grupos que apoyamos al gobierno y del propio gobierno

una adecuada gestión de las ayudas que nos ocupa lehenengo txanda hau amaitzeko

buenas tardes de nuevo a todos no deja de ser curioso que en la comunidad

administrativas estemos ahora debatiendo sobre la necesidad de ventanillas únicas de acelerar trámites de evitar ahogar a quien solicita

exigencias reiteradas y evitables y comento esto porque la solución al problema que aquí se plantea está en la propia administración en el reparto competencial interno en la desconexión entre las propias administraciones algo que por cierto debería haberse abordado con mucha anterioridad y que debería estar resuelto ya

y he de lamentar que una vez más vaya a ser tirada a la basura por quienes hacen del seguir haciendo su política de país seguir haciendo mal seguir sometiendo a tramitaciones

desde hace más de un año seguir repartiendo trocitos de competencias entre administraciones diferentes y desconectadas entre sí por quienes hoy van a aprobar seguir haciendo saben a ciencia cierta además que los problemas que hoy se plantean en esta cámara son reales

cada entidad que intenta obtener ayudas con las que salir a flote después de muchos meses con el agua al cuello sí claro que lo saben pero no les importa en absoluto

negocios que se han ido a pique y otros cientos que no saben qué va a ser de ellos trabajadores en erte o en paro familias sin recursos ahora mismo personas

es terrible saber que tu gobierno te da la espalda es terrible la certeza de que tu gobierno conoce los problemas y sabe que existen

la propuesta inicial y la enmienda del grupo popular ciudadanos tiene sentido más aún cuando está a punto de llegar al gobierno central

inyección económica insuficiente pero importante lo que desde luego carece del más mínimo sentido es la enmienda de los partidos del gobierno manifiestamente irresponsables

que las instituciones públicas ante la situación de crisis económica y sanitaria deberían de dar tres respuestas

potente escudo social que impulsamos desde el gobierno

ayuntamientos y todas las instituciones donde tenemos presencia la segunda es que la recuperación económica debería ser liderada por las administraciones públicas por el sector público y la tercera es que los sectores más afectados por el confinamiento por la crisis sanitaria y por la crisis económica que habían visto

perjuicios se tenía que compensar también de forma directa y ahora en este momento en el que parece que ya vamos hacia una recuperación tanto sanitaria como

seguimos defendiendo lo mismo pandemiaren bilakaera orain

y llevamos diciendo mucho tiempo que hay que virar de rumbo y apostar definitivamente por la ejecución prácticamente masiva de las ayudas directas e ir abandonando esa línea también masiva de avales crediticios que al final a largo plazo son una trampa para muchas pymes autónomos en este tiempo hemos visto que se ha ido incrementando el ratio de deuda de pequeñas y medianas empresas y también como decía

de las mismas por tanto todas las medidas todas y cada una de las medidas que son ayudas directas y urgentes son urgentes y especialmente en uno de los sectores que ya se ha hablado en la mañana de hoy y en otros momentos como

elkarrekin podemos unidas podemos en el congreso también en el gobierno del estado ha luchado para hasta el último momento para pelear por ese

en otra iniciativa en este mismo parlamento que las ayudas directas a empresas

de los cinco mil millónes iniciales que se habían propuesto y mucho más lejos de los dos mil quinientos

pero pensamos que es una inyección bastante importante de dinero público en la economía y sabemos además el

es tan grande se ha dicho esos doscientos dieciocho millónes posiblemente no sean suficientes para euskadi si tomamos en cuenta otro tipo de indicadores que no son los que se han tenido en cuenta a la hora de repartir las

siempre estaremos dispuestos a seguir apoyando y que se venga o que se aprueben nuevas medidas para que venga más presupuesto a euskadi pero también tenemos que tener en cuenta los criterios de solidaridad interterritorial que también tienen que tener su peso en esa negociación y que supongo que el señor gordillo estará de acuerdo conmigo en eso

el anexo uno del real decreto cinco barra dos mil veintiuno también se modificó entre otros por el impulso también de nuestro grupo en el gobierno del estado en este

que ejecute esas ayudas en todos los sectores que ese nuevo anexo también

permite se amplía en el acuerdo que ustedes han llegado con el grupo proponente se habla de forma genérica de ampliar los sectores

ya de una forma objetiva que son los que están en ese anexo esos doscientos dieciocho millónes además hay que sumar los más de quinientos millónes de euros en los erte y luego el complemento que también la señora pérez ha citado que

porque tenemos una experiencia bastante negativa para miles y miles de personas en el caso de la diputación foral de bizkaia del proceso de la hacienda

miles y miles de usuarios con quejas presentadas ante la

evidentemente todos los años y más en un año de pandemia en un año donde muchas personas además tienen que hacer declaraciones de la renta atípicas por las situaciones económicas que han vivido en primera

con garantías para la ciudadanía por tanto estamos de acuerdo con que se haya contratado personal en la iniciativa de una forma genérica se habla

se va a concretar pero nuestra reflexión es más a largo plazo eso que se está haciendo ahora de parche

estructural en las plantillas de la administración pública laguntza hauek kudeatzeko langile berriak kontratatu dira bai baina

no exigiendo en el año dos mil veintiuno que los documentos que están en manos de las administraciones se tengan que presentar una y otra vez por parte

pymes ni todos los profesionales y las profesionales que puedan acogerse a estas ayudas tienen la misma capacidad para gestionarlas sabemos los problemas que ha habido con el cierre de las oficinas públicas de atención presencial por tanto toda la facilitación para hacer los trámites online

bienvenida será en cuanto a la reflexión que también se hacía en la iniciativa original que también ha hablado la señora pérez de ella sobre la aplicación de las reglas

las entidades solicitantes pero bueno nosotros creemos que

un camino bastante tortuoso para las empresas y para los profesionales y las profesionales se tiene que adaptar a esta situación es verdad que ha habido cambios durante

los últimos meses pero pensamos que se puede abonar se puede caminar hacia una mayor

las personas solicitantes por tanto pensamos que es urgente que cuanto solucionar todas

que hemos detectado y que creo que hay un consenso amplio en que esas deficiencias han existido durante los meses de la pandemia durante el año y pico largo ya de la pandemia porque estas ayudas tienen que llegar de forma inmediata porque sabemos que cuanto más se demore estas ayudas también se va a demorar la recuperación

mayor recuperación económica también va a haber para todos no podemos seguir

esperemos que cuantitativo pero esperemos sobre todo que cualitativo también en todo lo que tiene que ver con la inversión pública pero cada mes cada semana cada día que se pasa sin ejecutar

sencilla en sus términos podemos estar de acuerdo con la literalidad de la misma pone deberes al gobierno nos hubiera gustado

más plazos pero bueno se ponen deberes en cuanto a la posibilidad de contratar más personal

forma de gestionar las ayudas de administración de esas ayudas y aunque haga falta más inversión y se lo seguiremos reclamando al gobierno vasco y lo seguiremos peleando también en el gobierno de españa pensamos que esta iniciativa

nosotros por nuestra parte queríamos reiterar quizá las dos principales ausencias que hemos visto en la propuesta

si no hay verdadera coordinación entre administraciones señorías todo tipo de medidas de pnl y de iniciativas que se lleven a cabo

porque no le vamos a facilitar la vida a los ciudadanos

y luego también echamos en falta la cuestión relativa a la evaluación

una evaluación de las medidas que se vayan adoptando en plazo relativamente cortos para poder ir corrigiendo también

la lucha contra el fraude y finalmente bueno la señora pérez ezquerra bueno la mesa ha sido muy generosa con la señora se ha dedicado a rebatir un poco una pnl que yo había retirado del orden del día de hoy pero bueno la discutiremos otro día seguramente y ya está sin más

ah sí una cosa nos gustaría poder votar los puntos uno dos y cinco

quisiera agradecer al grupo elkarrekin podemos izquierda unida el voto positivo a la enmienda transaccional que hemos alcanzado tanto el grupo socialista como nacionalistas vascos como euskal herria bildu y por otro lado

a lo largo del debate pues ya sentía yo que me faltaba algo

tiene el mismo vademécum para todas las intervenciones sin más y en cuanto a la evaluación señor gordillo

aplicaciones etcétera pero claro en cuanto a la efectividad de las medidas le voy a poner un símil usted que es profesor universitario es que este examen no lo estamos poniendo nosotros nosotros ponemos las aulas ponemos el personal

recogemos los exámenes pero luego la evaluación

duten herrialdeekin batez ere nuestras sociedades ya han pagado un alto precio

y esto no hace más que crecer día a día además hay grandes cantidades de dinero público detrás de la innovación

a toda la población y en todo el mundo y para ello es urgente cooperar y eliminar todos los obstáculos que lo impidan por todo ello el parlamento vasco bat insta al gobierno de españa a cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan fabrican en cantidades suficientes

a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo esto abarca prestar asistencia técnica y económica a otros estados colaborar en mecanismos establecidos por la oms para

tales como el acelerador del acceso a las herramientas contra la covid diecinueve y su pilar